buenos días el tema que trae mi grupo aquí creemos que es un tema que incluso

haya habido distintos puntos de vista

por qué porque estamos hablando de los especialistas de apoyo educativo los especialistas de apoyo educativo

y yo creo que lo van a ser más en el futuro una pieza clave en la educación por qué nosotros tenemos desde luego el gobierno puede ser que tenga datos más exactos de unos ocho mil estudiantes de los trescientos y pico mil estamos hablando siempre de la enseñanza obligatoria

estudiantes con algún tipo de dificultad de trescientos y

y entonces al mismo tiempo creo que todos los grupos estamos convencidos en que la equidad

es fundamental y en qué consiste esa equidad pues esa equidad consiste en dar a cada persona aquello que necesita para que luego podamos alcanzar una igualdad plena lógicamente estos ocho mil y pico niños y niñas estudiantes

tienen necesidades especiales y hay que atenderlas y por eso para verdaderamente conseguir un sistema educativo de calidad

en instrumentos claves en nuestra sociedad el pasado mes de mayo dos especialistas de apoyo educativo

con muchos años catorce quince años de experiencia a sus espaldas y que representaban un colectivo de

y nos explicaron su problemática nos explicaron las formas de trabajo y aquellas cosas que podríamos entre todos mejorar lo primero que nos dijeron es que

pues empezaron con una consideración meramente de auxiliar y si eran meramente auxiliares

recoger a esos niños en el domicilio llevarlos a los centros

y devolverlos a sus domicilios pero claro la profesión de especialista de apoyo educativo va mucho más allá

requisitos mucho más profundos que esa mera capacidad auxiliar son personas que tienen que hablar lenguaje de sordos son personas

son personas que tienen que tener conocimientos sobre

que es como se llama en estos momentos a todas estas criaturas porque la problemática es muy amplia entonces son trastornos del espectro autista son personas que por supuesto tienen que cumplir los requisitos de bilingüismo por lo menos y son personas sobre las que recae

el avance tanto pedagógico y docente como el bienestar social de esos niños en sus grupos

de padres que tienen criaturas en estos grupos recuerdo especialmente

era que esos niños que tienen desde luego sus capacidades emocionales no solamente perfectamente desarrolladas sino incluso a veces

porque no están compensadas por otro tipo de malicias o por otro tipo de estrategias para sobrevivir en el grupo que

veían como esos niños iban siendo cambiados de aula perdían su grupo perdían sus compañeros

son vitales porque pueden acompañar a esa criatura y ayudarle a no quedarse aislado y a progresar con el grupo

sintiéndose incluidos y acompañados este es un ejemplo sencillamente de la importancia de su labor y qué dificultades veían ellos en el desempeño de su función bueno vamos a ver al ser considerados o tratados porque ya el decreto de dos mil cuatro

consideración de auxiliar y les daba un empoderamiento algo mayor

ese empoderamiento tanto a los berritzegunes como a los colegios pues veían por ejemplo cosas como que

en las reuniones con los padres los padres de esas criaturas se reunían con el tutor y el especialista de apoyo educativo

probablemente es el que más conocía a la criatura porque se pasaba con ese niño o con esa niña

no tenía acceso a hablar con los padres o incluso niños que estaban siguiendo un tratamiento y cuya validez la validez de ese tratamiento la eficacia podían ellos valorar mejor mejor que nadie por eso porque estaban con ellos todo el día no tenían acceso tampoco a ese seguimiento no se les incluían

es decir era por profesionalidad era casi una lucha en solitario y una lucha en solitario como digo de un colectivo clave para alcanzar la equidad en la educación

de esa comparecencia que pidió nuestro grupo en la comisión nosotros desarrollamos esta proposición no de ley que hoy traemos aquí es cierto

que la consejería no ha estado de brazos cruzados y recientemente ha emitido un decreto pero es un decreto

que sobre todo trata de sus condiciones laborales lo cual está muy bien porque desde luego

pero la queja que trajeron los especialistas de apoyo educativo no fue una queja laboral no fue una queja económica no fue una queja de horarios fue una queja profesional profesional por eso nosotros

en esta proposición no de ley que traíamos pedíamos

un nuevo protocolo de actuación que los

un especialista de apoyo educativo interviene se sienta suficientemente empoderado para hablar de la persona del niño o

en el mayor desarrollo tanto pedagógico como social de esta criatura eso es lo que nosotros pedíamos hemos llegado a una transaccional con los grupos que apoyan

porque desde luego los grupos que apoyan pedían que se pusiera de relevancia y es justo que se haga la labor que ha hecho la consejería de educación

a una mejora de las condiciones de los especialistas de apoyo educativo esa era su enmienda pero nosotros no podíamos aceptar esa enmienda tal cual si no se añadía una parte en la que hubiera una petición al gobierno de ese empoderamiento profesional

de ese conocimiento del expediente de la criatura incluso por supuesto guardando como no puede ser de otra forma

que conoce datos personales de alguien pero que tuviera incluso acceso a esos tratamientos que tienen los niños porque lo cierto es que la persona que mejor puede evaluar

satisfactorios o no es esa persona que se pasa con esa criatura todo las horas lectivas también queríamos que

lo cual dependía mucho del centro había unos centros que lo permitían pero había otros centros que no lo permitían decían no los padres solo hablan con los tutores

hacía las profesoras y profesores en absoluto pero hay que pensar

o un profesor que tiene pongamos veintidós niños veintiuno niños en el aula y tiene tres niños que necesitan esa ayuda especial pues lógicamente teniendo un especialista de ayuda especial descargará del conocimiento del progreso y de la socialización de esos niños que necesitan una ayuda extra y tenderá a concentrarse en los otros dieciocho diecinueve que pueden progresar estadísticamente normal de forma normal estadística

sentar un criterio de lo que es normal o no sino de lo que estadísticamente es normal y claro a la hora de tratar con los padres de esos niños que

es el que más conoce a la criatura el que más conoce incluso hay muchas veces que los centros piden a estos especialistas que desarrollen

a estas criaturas o en otros casos cuando son niños que vienen de culturas diferentes que desarrollen un plan de trabajo para que estos niños puedan con el tiempo acabar integrados en la clase

qué necesitan los especialistas necesitan estar empoderados necesitan estar empoderados actuar con autoridad con responsabilidad y en comunicación con todos los adultos

por eso porque recoge las dos cosas primero como es lógico reconocer la labor del departamento de educación en lo que ha hecho respecto a los especialistas de apoyo educativo pero que sobre todo trata de condiciones laborales

ese empoderamiento para estos profesionales alcanzado este consenso hemos firmado la transaccional y por tanto la votaremos a favor

hoy comenzamos este pleno debatiendo sobre un colectivo

desde elkarrekin podemos en otras ocasiones está siendo una pieza clave y fundamental para el desarrollo de un sistema educativo vasco realmente

inclusivo hablamos del colectivo de los y las especialistas de apoyo educativo un colectivo de educadores y educadoras que con su labor diaria una labor esencial trabajan para garantizar una escuela pública vasca verdaderamente inclusiva porque el papel lo aguanta todo

con que la palabra inclusiva se refleje en nuestras leyes ni que se repita una y otra vez con eso no nos basta la inclusión real necesita apoyos apoyos recursos y también reconocimiento desde la administración educativa la labor que realizan
los y las especialistas de apoyo educativo y el conjunto de profesionales isiltasuna mesedez

equitativo de igual manera que es imprescindible que este gobierno apoye tanto al colectivo docente como al personal educativo de los centros

este colectivo trabaja con el alumnado que tiene necesidades educativas especiales y con el alumnado que necesita de apoyo educativo tanto dentro como fuera del aula

es garantizar que este alumnado tenga un desarrollo integral saludable les facilitan el acceso al currículum escolar les ayudan a desarrollar la máxima autonomía posible en diferentes ámbitos a promover y desarrollar sus relaciones sociales

es esencial para poder ofrecer una educación pública y de calidad para todos y todas y que no deje a ninguna persona atrás por eso

se merece que este parlamento reconozca su labor diaria como profesionales y por ello el primer punto de nuestra enmienda a la totalidad se ha centrado en este aspecto en instar al gobierno vasco a reconocer la labor esencial de los y las profesionales especialistas de apoyo educativo como educadores para garantizar una escuela berbotsa yo sigo cuando el resto por favor respete ya eskerrik asko

desde elkarrekin podemos creemos que este colectivo se merece que este parlamento reconozca su labor diaria como profesionales

la labor esencial de los y las profesionales especialistas de apoyo educativo como educadores para garantizar una escuela vasca verdaderamente inclusiva pero además creemos que no solo se merecen reconocimiento los y las especialistas de apoyo educativo un colectivo concreto

sino que también es necesario reconocer la labor del conjunto de profesionales que componen el colectivo de los y las educadores de educación especial es decir fisioterapeutas intérpretes de lenguas de signos

es por ello que aprovechamos esta intervención para también reconocer

de estas educadoras entre todos y todas los y las educadores de educación especial hacen posible caminar hacia un sistema educativo realmente equitativo hacen posible que cada niño y niña reciban el apoyo que necesitan específica y exactamente así mismo creemos que este colectivo se merece un reconocimiento explícito porque a menudo se trata de un colectivo invisible invisible dentro del conjunto de la comunidad educativa

ya que ni siquiera disponen del derecho a voto en los claustros en la mayoría de centros espacios donde se adoptan decisiones que les afectan de forma directa un colectivo que aunque hoy en día y en términos generales ya se le reconoce como educadores y educadoras sigue siendo habitual

auxiliares o ayudantes pasemos a los datos y a lo que recoge la normativa vigente según los datos recogidos en el primero capítulo del último informe del consejo escolar de euskadi nos encontramos ante una problemática

el plan estratégico de atención a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva durante los cursos dos mil trece dos mil catorce y dos mil catorce dos mil quince constituye la referencia

para atender al alumnado con necesidades educativas especiales en este plan se considera alumnado con necesidades educativas especiales a aquel que presenta discapacidad y o trastornos graves de conducta sin embargo como es sabido

constituye solo una parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo este concepto es más amplio y da cabida además al alumnado con dificultades de aprendizaje al de altas capacidades intelectuales al de incorporación tardía al sistema educativo a aquel con necesidades específicas por condiciones personales

social qué es lo que ocurre entre los recursos posibles cuando resultan insuficientes todas las medidas ordinarias se encuentran las adaptaciones curriculares

para el alumnado de necesidades educativas especiales y posteriormente en dos mil doce mediante unas instrucciones de la viceconsejera de educación

especifica de apoyo educativo es al alumnado con necesidades educativas especiales al que prioritariamente siendo susceptible de ello se le asignan recursos específicos

en el informe no todo este alumnado requiere los mismos recursos ni en relación al tipo ni al tiempo de atención que necesitan de ahí la dificultad

y los referidos a los recursos asignados ya que dichos recursos varían

de necesidades educativas especiales representando un dos coma diecinueve por ciento del alumnado desde el nivel de dos años

lo que supone un incremento del cero coma cinco por ciento respecto al curso anterior

sobre el tipo de discapacidad los incrementos más significativos se producen en el alumnado con discapacidad motora

un quince coma siete por ciento siendo el incremento medio total de un nueve por ciento en el curso dos mil catorce dos mil quince

ahora bien si nos referimos al conjunto del alumnado de necesidades específicas y apoyo educativo se observa que hay un conjunto de alumnos y alumnas sin determinar

escolarizados a niveles iniciales que no cuenta con un diagnóstico definitivo los datos nos indican

de apoyo educativo es de casi el quince por ciento entre ambos cursos por ello el consejo escolar de euskadi aun costando el esfuerzo realizado

solicita la adecuación de los mismos a los conceptos propuestos

a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva y en concreto solicitan la diferenciación clara entre alumnado con necesidades educativas especiales y alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la misma línea tanto en el nuevo decreto por el que se establece el currículo de la educación básica como en el citado plan estratégico se introducen los conceptos de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y el de escuela inclusiva

no se encuentran definidos en la normativa vigente el decreto ciento dieciocho barra mil novecientos noventa y ocho del veintitrés de junio de ordenación de la respuesta educativa al alumnado

educativas especiales en el marco de una escuela comprensiva e integradora así pues el consejo solicita al departamento la actualización de la normativa en vigor

de las necesidades específicas de apoyo educativo en el marco de una escuela inclusiva igualmente llama la atención sobre la necesidad de regular en esa nueva norma las condiciones y consecuencias de la aplicación de la adaptación curricular

de su interpretación en dos marcos distintos la orden de mil novecientos noventa y ocho y las instrucciones del dos mil doce vayamos con las funciones el objetivo

se rigen bajo el actual convenio colectivo para el personal laboral docente y educativo dependiente del departamento de educación

ya recoge las funciones de los y las especialistas de apoyo educativo por lo tanto no creemos que sea necesario la elaboración de un reglamento que defina la actividad de los especialistas de apoyo educativo

que estas funciones deben de ser revisadas pero desde elkarrekin podemos consideramos

las condiciones laborales es decir lo que debe revisarse es el conjunto del convenio un convenio que lleva catorce años sin revisarse catorce años en nuestra enmienda realizada el veintisiete de febrero en el punto cuatro instábamos al gobierno vasco

a una mesa sectorial de negociación en la que se abordase la renovación del convenio colectivo que como hemos dicho lleva sin revisarse desde el dos mil cuatro

que ha supuesto un paso importante en la mejora de las condiciones laborales del colectivo es decir

de nuestra enmienda inicial sin embargo consideramos que esto es solo un paso más y desde elkarrekin podemos creemos que lo que realmente hace falta es seguir dando pasos ya que al fin y al cabo la propuesta planteada

en este mismo sentido en el punto cinco de nuestra enmienda inicial instábamos al gobierno vasco a convocar oposiciones en este sector educativo que en el caso del personal especialista de apoyo educativo no se convocan desde el dos mil siete hace once años y afortunadamente hemos comprobado también

que en los próximos presupuestos se recoja esta inversión en definitiva todas y todos educamos cada cual desde su lugar y a través de sus conductas y prácticas diarias

sino todos los miembros de la comunidad educativa eso incluye a las familias los docentes las direcciones de los centros

y todo el colectivo de educadores y educadoras de educación especial termino ya

con que la diversidad enriquece pero todas sabemos también que para atender a la diversidad debemos contar con un personal motivado cuidado y que trabaje en unas condiciones laborales

es nuestra obligación apoyar desde este parlamento al colectivo docente y educativo reconociendo su trabajo analizando su realidad adaptando la normativa vigente y mejorando sus condiciones de trabajo no podemos seguir como hasta ahora

cambios a nivel estructural normativo y laborales mila esker eskerrik asko

popular nos trae una proposición no de ley relativa a la elaboración de un reglamento que defina la actividad de los especialistas de apoyo educativo ya tuvimos ocasión en la comparecencia en la comisión de educación el treinta de mayo

de especialistas de apoyo educativo comparecieron para informarnos y explicarnos su situación de primera mano

procedentes de las dos redes educativas de la pública y de la concertada

porque en teoría son meros asistentes del alumnado de necesidades educativas especiales denominados especialistas de apoyo educativo pero en la práctica su tarea es otra no se les considera como docentes y tienen además dificultades a la hora de realizar su labor

a veces porque ni siquiera se les informa lo cierto es que las explicaciones que nos ofrecieron nos sirvieron a todos

y tener una visión certera en lo que respecta a su desarrollo laboral lo primero que queremos hacer aquí desde el grupo socialista es un reconocimiento a la labor y el trabajo

de diversos centros educativos de euskadi porque desde luego no parece que sea tarea fácil

se destina a niños y niñas con tan diversas y dispares necesidades y esa es una realidad en la que tienen que enfrentarse día a día la realidad es que el panorama educativo

y se va modificando con el tiempo los alumnos que antes demandaban este apoyo o ayuda no son los mismos no solo podemos pensar que esta modalidad la demandan niños y niñas con autismo o con síndrome de down

la realidad del día de hoy va mucho más allá tenemos un alto porcentaje de alumnos extranjeros

en los colegios públicos especialmente donde hay una mayor tasa de emigración

llegan a las aulas sin saber nada de castellano y menos aun de la segunda lengua oficial que tenemos en el país se les mete en aulas donde se hablan tres idiomas

y necesitan de ese apoyo de los especialistas tener alguien que les ayude y les enseñe en ese periodo de transición

aun así es verdad que existe una diferencia entre la red pública y la red concertada en la red pública no son tampoco reconocidos como docentes aunque sí tienen derecho a horas no lectivas en las que se puedan organizar y preparar el material

por lo que su tarea se convierte aun en más compleja al no saber siquiera ni el nivel educativo en el que están tienen la dificultad de no conocer la realidad personal de cada alumno

reivindicación que el grupo socialista comparte y que entendemos como lógica son contratados por el gobierno vasco aunque en realidad

pero cada centro tiene la posibilidad de decidir ampliar esas necesidades o delimitarse a lo establecido por el berritzegune existen colegios que contratan personal más allá de lo estipulado y que no entra dentro de la subvención y otros centros que deciden no contratar más personal

y esto lo que al final crea es una desigualdad entre los alumnos que tienen necesidades especiales

que un especialista se ocupe de cuatro alumnos o que de esos mismos alumnos se ocupen dos especialistas las funciones y condiciones de trabajo del personal especialista se regulan por el convenio colectivo para el personal laboral docente y educativo dependiente del personal del departamento de educación del gobierno vasco

para su interpretación estudio y vigilancia corresponde a la dirección del centro establecer los horarios y el control de los mismos la asistencia las licencias etcétera y como ya he mencionado es competencia de los berritzegunes establecer

a desarrollar con el alumnado todo esto está recogido en las instrucciones de la dirección de innovación y del director de gestión de personal para el personal especialista de apoyo educativo para el curso escolar dos mil diecisiete dos mil dieciocho además refleja que en lo que respecta la relación con las familias este personal en colaboración con el equipo docente informará en el ámbito de su competencia a los representantes legales del alumnado con la periodicidad que se establezca

a este personal dentro de las redes educativas y dentro de los centros a los que pertenecen porque lo cierto es que la mayoría de sus reivindicaciones son perfectamente realizables y además se debe de trabajar como un equipo por el bien de nuestros alumnos

la calidad educativa de los niños con diversas discapacidades primando la atención a estos y sobre todo porque entendemos que es nuestro deber hacer una escuela inclusiva no solo una escuela integral y con esta tarea comenzó por ejemplo el consejero socialista josé ramón recalde

con los centros específicos de educación especial que había entonces y sacarlos a las escuelas haciendo así una escuela inclusiva evidentemente esto ha sido tarea y mérito el desarrollar esta medida y el permitir que la escuela avance en la inclusividad del alumnado y nuestro deber es continuar con esta tarea sabemos además

con el departamento de educación la modificación del decreto que establece la relación de puestos de trabajo del personal laboral no docente

especiales en los centros docentes de euskadi con esta modificación se crean cincuenta nuevos puestos todos ellos de la categoría de especialistas de apoyo educativo

las cincuenta nuevas plazas creadas se añaden a las ciento veintidós plazas aprobadas en la relación de puestos de trabajo del dos mil diecisiete y responden a la senda de acuerdos logrados con la representación sindical en la mesa de negociación de educación especial esas nuevas plazas ya de carácter estructural en la plantilla lo cual es importante

del departamento de educación por lo tanto creo que aunque no sea la totalidad de lo demandado creo que la enmienda que vamos a aprobar hoy constituye

ona da oso ona como decía en euskera el trabajo realizado y las negociaciones llevadas a cabo han permitido

el diálogo y la negociación en las diferentes mesas sindicales son las herramientas que hacen posible acordar mejoras laborales que redundan a su vez en una mayor calidad

educativo esta es la vía por la que tenemos que seguir trabajando por la vía del diálogo decía la consejera

debemos poner en valor la importancia de la negociación y la consecución de acuerdos con la parte sindical el diálogo y la negociación en las diferentes mesas sindicales son las herramientas que hacen posible

en una mayor calidad del servicio que se presta a la sociedad hau horrela izanda talde popularreko

bueno vamos a ver nuestro grupo va a intentar sobre todo en este tema yo creo que en general no

nos parece que es lo adecuado y más en este tema en el que yo creo que de fondo hay

algunos de los reproches que se nos han hecho se nos dice

no hemos hablado de otros especialistas de los fisioterapeutas de los terapeutas ocupacionales

a ver por qué es esto porque en estos momentos nos parece que meter

en la misma bolsa puede perjudicar el tratamiento

se ofrece como no puede ser menos a estudiar la casuística de estos otros grupos y no dejarlos a parte y no dejarlos a parte

tocaba especialistas de apoyo educativo y no queremos su casuística diluirla

uno por uno vamos a ver luego también se nos ha reprochado que no nos hemos ocupado de la situación más gravosa de los especialistas de apoyo educativo en los centros concertados que es

porque nosotros no metíamos esta situación en la parte resolutiva la poníamos en la parte explicativa como un ejemplo más pero lo que no hay duda es que en las conversaciones que están en marcha

al tratar las situaciones laborales en el marco del nuevo convenio se pueden hacer diferencias por qué no se pueden hacer diferencias porque no es como el caso de los profesores los especialistas

están todos contratados por el gobierno vasco y de verdad yo tengo en suficiente estima a los sindicatos como para saber que en el marco de esas negociaciones no van a negociar una doble vía

para un colectivo único triste sería me llamaría mucho la atención

que están contratados directamente por el gobierno vasco vayan a la red pública o vayan a la red concertada y que esos sindicatos sean capaz de hacer dos grupos bueno estos mejores y estos peores no desde luego nosotros

toda la razón o sea que esté todavía vigente un convenio de dos mil cuatro pues es cuanto menos chocante por no poner un adjetivo más fuerte es chocante esperemos que esté en vías de negociación

se abre la vía para una mesa paritaria en la que se van a discutir estos temas pero

por no haber tratado el tema del convenio no quiero porque nosotros en nuestra proposición no de ley

que presentó el colectivo que presentó el colectivo no presentaron en su comparecencia ni demandas laborales ni demandas de condiciones técnicas

no no fueron mucho más generosos lo que nos pidieron es que atendiéramos las dificultades profesionales que tenían para poder hacer mejor su trabajo y nuestra proposición no de ley atiende a esa expectativa que nos plantearon y desde luego

no bienvenido bien hallado por fin después de tantos años

un convenio que no creo que discrimine para un mismo grupo de trabajadores contratados por una misma patronal no lo creo pero aquí nuestro grupo de lo que se trata es de las condiciones

profesionales desde luego seguiremos vigilando la situación y vigilaremos los presupuestos del año que viene para que verdaderamente

para que las condiciones profesionales mejores

lo que salga del convenio que esperemos que llegue pronto y que sea satisfactorio gracias

que hay un consenso sobre la necesidad de reconocer

las educadoras y a los educadores de apoyo a los especialistas de apoyo educativo y entiendo que esa es una cuestión en donde todos los grupos parlamentarios llegamos a un consenso sin embargo señora de bengoechea a mí me resulta

de pedir un reconocimiento para las especialistas de apoyo educativo y

reconociendo el papel de la administración que está dando pasos como ya hemos dicho nosotras en nuestro discurso inicial pero es su responsabilidad

no lo comprendemos y no entendemos cómo ha variado en tan poco tiempo además usted habla constantemente de las reivindicaciones que en una comparecencia del treinta de mayo en la comisión de educación una serie de condiciones profesionales presentó un colectivo a nosotras no nos consta que desde la red pública esa plataforma exista que ni sea real ni esté constituida

a pesar de que podemos compartir algunas de las cuestiones que evidentemente se dijeron comisión ha quedado creo que muy claro que para nosotras es muy importante que el objetivo y que además así consta en la enmienda de transacción que hemos firmado con eh bildu y agradecemos además porque sí partimos que hay un consenso hay una necesidad

un intento de acordar por parte de todos los grupos es evidente

una cosa que no tiene nada que ver con lo que presentó por eso nosotras incidíamos mucho en el primer punto que tenía que ver con el reconocimiento a la labor esencial de las profesionales especialistas de apoyo educativo como educadores para garantizar una escuela vasca verdaderamente inclusiva hemos dejado muy claro en nuestro discurso anterior

porque parece que no hace falta cambiar un modelo y nosotras entendemos que sí y sobre todo

de la enmienda que hemos transado que hablaba de continuar trabajando en la mejora de la calidad del servicio de los y las especialistas de apoyo educativo y sus condiciones de trabajo con el objetivo

de renovar el convenio de dos mil cuatro en el marco del acuerdo de la mesa de negociación del convenio colectivo del personal laboral docente y educativo del departamento de educación de fecha

es evidente que se han dado pasos pero nosotras entendemos que hay que dar más pasos y que hay que ir y que hay que ponerse como objetivo concreto no seguir no continuando o sea es evidente que claro

pero creemos que hay que poner concretamente y que para que nosotras

habían hecho tenían que especificar que el objetivo es la renovación del convenio del dos mil cuatro

que la cuestión fundamental es esa por eso nosotras como ya

hemos firmado esta propuesta creemos que es la adecuada lamentamos además mucho mucho porque en mi caso yo conozco

la realidad de estas personas y creo que su labor es indiscutible creo que su labor es esencial creo que además es un colectivo que está

muy necesario para todas las personas con necesidades específicas y por ello lamentamos que ustedes

eskerrik asko ubera andrea euskal sozialistak pastor jauna bertatik zurea da hitza sí desde el escaño si me permite
hombre yo creo que tengo que decir que había y sigo pensándolo mimbres suficientes para haber podido forjar hoy un gran acuerdo sobre este tema no y lamentamos profundamente que esto no haya sido posible porque más allá

reproches de unos grupos a otros creo que hay un fondo común en la iniciativa porque aquí no hemos venido a hablar de todos los problemas de la educación sino de un problema concreto y creo que en ese sentido en el del reconocimiento y la mejora

había un consenso prácticamente unánime y por lo tanto lamento que no haya sido posible pero en cualquier caso nos parece que el acuerdo que

es un acuerdo que en cualquier caso es beneficioso para este colectivo y mejora objetivamente su situación eskerrik asko pastor jauna

labur labur señora garcía larrimbe por supuesto que hay que seguir dando pasos ese es el fin del gobierno siempre pero un paso

y el siguiente será el que se está preparando en el que se está trabajando ahora se va a por el siguiente pero dónde en la mesa de negociación ese es el foro para eso está y para eso hay que sentarse a hablar y por desgracia hay algunos y algunas que todavía no están dispuestos a ello

pastor en relación con que efectivamente hoy estamos tratando un tema concreto y especifico porque efectivamente si abrimos el debate

vuelvo a decir que pensamos que es buen acuerdo el de hoy

coloquialmente esaten den un a dónde vas manzanas traigo horrek

en nombre de la coalición de nuestra coalición elkarrekin podemos la transacción

presumiblemente va a ser aprobada por este parlamento esta mañana pretende derogar el decreto del que ha hablado la señora

que suponía una serie de recortes en los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores

y además plantean nosotros planteábamos a través de nuestra enmienda instar al gobierno a que presentase un plan para que las y los docentes no universitarios que ya se han jubilado después de aquel decreto de recortes puedan recuperar las cantidades económicas

con aquel recorte aquel decreto nueve barra dos mil doce era un decreto aprobado por el gobierno entonces socialista de patxi lópez un decreto

en una serie de políticas que estaban aplicando diferentes gobiernos como en el conjunto del estado como en diferentes países con la justificación o con la excusa de la crisis

una crisis económica del sistema capitalista que desde luego no habíamos generado las y los trabajadores

con una serie de políticas dictadas precisamente por quienes trabajan en organismos internacionales al servicio de los interés del capital y al servicio también de quienes habían generado la propia

este recorte a través de aquel decreto nueve barra dos mil doce se plasmaba en una serie de pérdidas de derechos entre las que destacan

pérdida de los complementos a la incapacidad temporal una reivindicación histórica de la clase trabajadora y que para el caso de este colectivo había sido ya conquistada suponía la perdida

anticipada por jubilación a los sesenta años una

que permite al sistema público garantizar una renovación de la plantilla pública y unas mejores condiciones de trabajo porque también una jubilación es una mejora de las condiciones de las y los trabajadores y también se cargaba una cosa que me parece muy importante que es el

que también fue una conquista histórica en su momento y que para nuestro grupo parlamentario es muy importante porque es una de esas medidas que vienen a repartir el empleo de las que solemos hablar

estos recortes a través de aquel decreto se hacían con la justificación famosa de estas políticas que buscaban teóricamente la reducción del déficit del déficit público a través fundamentalmente de recortar derechos sociales

y a través de recortar derechos de las y los trabajadores tanto del sector privado como del sector público políticas que se vinieron aplicando por diferentes gobiernos por el gobierno

después por el gobierno popular en el conjunto del estado pero que también aquí

del señor iñigo urkullu hasta tal punto estas políticas

de la noche a la mañana el partido popular y el partido socialista en pleno verano precisamente para poder impulsar este tipo de políticas y ese es en el marco

que hoy este parlamento va a instar a derogar nuevamente porque ya este parlamento en el propio año dos mil doce insto

a su derogación un decreto además que supuso la ruptura de los acuerdos con los sindicatos que ya se habían firmado en el año dos mil diez

a espaldas de los sindicatos sin negociar con los sindicatos y también contra la opinión mayoritaria como decía de este parlamento que aprobó la derogación

de aquel decreto lo aprobó con los votos entre otros

y por lo tanto nuestra coalición elkarrekin podemos vamos a seguir manteniendo la misma posición que mantuvimos entonces por la derogación de ese decreto que supone recortes de derechos de las y los trabajadores

sobre la posición del partido nacionalista vasco porque nos parece una posición

porque en aquel momento como ya ha explicado la señora ubera

y votaron instar al gobierno a derogar aquel decreto

y hoy gobernando en coalición con el partido socialista de euskadi siguen manteniendo aquellos recortes y por lo tanto pues eso nos parece una hipócrita pensamos que si realmente se creían aquello que votaron ya deberían haber derogado aquel decreto y haber negociado también la devolución de las cantidades no cobradas por las y los profesores nosotros pensamos desde luego que si teníamos argumentos en el año dos mil doce para decir que no se debía poner en marcha este decreto y que había que derogarlo que hoy si cabe tenemos muchos más argumentos porque una de las excusas por las que se aprobó o el gobierno entonces del partido socialista

fruto de los problemas económicos de la crisis que no había presupuesto suficiente y que

que estos trabajadores públicos se tenían que apretar el cinturón y hoy sabemos y nos dicen

nos dicen que ha aumentado la recaudación pública y nos dicen que vamos por el buen camino económicamente hablando entonces cuál es la justificación para mantener una medida que ya en su día se nos presentó como coyuntural debido en nuestra opinión no hay ninguna justificación posible nosotros pensamos que la enmienda que han presentado de manera conjunta el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

iniciativa que necesita aprobar este parlamento en primer lugar porque prácticamente solo hace referencia a una de las partes

a los que metió mano aquel decreto y pensamos que por dignidad hay que derogar aquel decreto que suponía una serie de recortes generales en segundo lugar

apelan a una disponibilidad presupuestaria futura y eso deja las manos libres al gobierno para decirnos

que no hay disponibilidad presupuestaria porque las prioridades para el gobierno pueden ser otras y por lo tanto aunque se aprobase esa iniciativa propuesta hoy por el partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi

mojado y no valdría absolutamente para nada y además y sobre todo también porque no incluye la retroactividad es decir la mayoría de profesoras y profesores que se han jubilado

seguramente se quedarían sin recibir las cantidades que eran un derecho que fue recortado de manera unilateral por un gobierno con la excusa

por eso no nos parece una enmienda oportuna nos parece que la transacción a la que hemos llegado desde los grupos de la oposición con toda nuestra diversidad ideológica es la iniciativa que tiene que aprobar este parlamento y es la que corresponde hoy y también llamaré la atención sobre una última cuestión que nos preocupa aunque se apruebe esta

para sospechar de la voluntad del gobierno de cumplir el acuerdo del parlamento porque como ya hemos dicho anteriormente este parlamento ya aprobó

y diferentes gobiernos primero del partido socialista después del partido nacionalista vasco y ahora del conjunto del partido nacionalista vasco con el partido socialista han hecho oídos sordos a aquel mandato parlamentario y por lo tanto

de que aunque aprobemos hoy esto el gobierno vasco nos vaya a escuchar y por eso nosotros aprovechamos para decirle al gobierno vasco para pedirle al gobierno vasco en esta sesión

apruebe la mayoría parlamentaria de este parlamento que no ningunee la voluntad mayoritaria de un parlamento que representa a las y los electores de euskadi le pedimos que atienda lo que hoy se apruebe y que ponga fin a estos recortes

muchas gracias señora presidenta saludar a los afectados del asunto que nos trae hoy aquí yo creo que sí hay que hacer un poco de historia y porque estamos aquí y hay que recordar que estando

que quedarán suspendidos los derechos de los funcionarios teóricamente para ese año y esto se desarrollaría mediante un decreto ese decreto que aprobó el gobierno socialista de la época el treinta y uno de enero

una de las cosas que se plantea suprimir de una vez por qué se hizo esto en aquella época

ubicarse en el tiempo era el año dos mil once el año dos mil doce los ingresos fiscales caían estábamos en plena crisis económica y esta fue una de las muchas medidas

intentar cuadrar los presupuestos nosotros no vamos a defender ni vamos a decir si los acuerdos del gobierno vasco

nunca hemos negociado esos convenios

cuando alguna vez alguien dice bueno pero es que esos derechos que se ponían eran demasiados oiga los que firmaron los que lo firmaron

ese mismo año en el dos mil doce hubo una moción de aralar que salió aprobada pidiendo la derogación de ese decreto y yo quiero recordarle nacionalista vasco que el planteamiento que dijo es que era una barbaridad ese artículo que se metía en la ley de presupuestos porque jamás desde el año mil novecientos ochenta y dos el gobierno vasco había incumplido acuerdos con los sindicatos

del propio gobierno vasco incluso llegó a plantear un incidente recuerdo diciendo que eso era una enmienda a la totalidad del presupuesto

y ese dinero quedaba al margen de los presupuestos cosa que algunos no entendíamos que era así

de alguna forma digamos lo que se ha dado en llamar recortes sociales luego llegó el gobierno del pnv

todos los años ahora estamos en el gobierno pnv pse que lo sigue manteniendo el último artículo

y nosotros sí tenemos que decir que en fin las cosas han cambiado

sustancialmente no estamos en el dos mil once no estamos en el dos mil doce estamos en el dos mil dieciocho es evidente que la economía no es la misma es evidente que el gobierno vasco ya no tiene los problemas que tenía

empezaron en el año dos mil nueve con una caída de recaudación del veinte por ciento de lo previsto no estamos en esa situación

y nosotros aquí queremos decir un par de cosas para que queden claras por lo menos desde la postura de nuestro grupo este no es un derecho recortado como alguien ha dicho

anulado derogado o revocado ni recortado es suspendido como se suspendió la paga extra de un año y luego se fue recuperando durante los ejercicios siguientes y por lo tanto esto es una deuda que tiene el gobierno vasco con quienes han sido funcionarios de este gobierno vasco

como deuda en ningún sitio pero al fin y al cabo es un derecho que se suspendió por unos motivos esos motivos ya no existen por lo tanto lo que procede es devolverlo

del gobierno vasco esté gobernando el que esté gobernando pero es que están gobernando los que son responsables de esta situación y en la propuesta que nosotros hemos hecho

a negociar con los afectados y los afectados no son los sindicatos porque los afectados ya no están sindicados bueno no sé si estarán sindicados están jubilados o sea los sindicatos evidentemente no les representan les podrá representar adostuz o la asociación que ellos quieran o planteen y nosotros qué les décimos al gobierno vasco oiga siéntese a negociar con ellos

por lo que nosotros hemos hablado con ellos están abiertos a hacer

se plantee para llegar a un acuerdo y solucionar este tema esto es lo que se le insta al gobierno en esta proposición no de ley que se siente a negociar

esos derechos suspendidos que creo que es bastante simple y que se entiende bastante bien y que por cierto afecta

que están ya afectadas que también parece que se nos olvida de qué estamos hablando y si el gobierno

es incapaz de llegar a un acuerdo o de sentarse a negociar

porque esto es una responsabilidad del gobierno no es una responsabilidad del parlamento antes o después el gobierno tendrá que devolver ese dinero y cuando nos vamos a la enmienda del gobierno

y previa negociación con la representación sindical que ya he dicho que no son los que precisamente representan a los afectados que están aquí

y siempre que la disponibilidad presupuestaria y la estabilidad financiera lo permita oigan pues

si disponibilidad presupuestaria el año dos mil diecisiete hemos batido el record de recaudación

así como en el dos mil nueve fue el desastre de recaudación en el año dos mil diecisiete

sin contar las liquidaciones del cupo más de setecientos millónes datos de enero a marzo del gobierno

de nueve coma seis por ciento de incremento de recaudación es evidente que no estamos en el dos mil once ni el dos mil doce y es evidente que la disponibilidad

si el gobierno quiere existe porque incluso está teniendo más ingresos de los previstos para pagar los gastos en el presupuesto por lo tanto existe esa disponibilidad financiera y aquí lo que falta es

si de verdad hay voluntad política de los socios del gobierno vasco de solucionar o de empezar a solucionar este tema que es un tema que cada año va engordando

que son hoy y la bola crece llegará un momento que se acabará ya sabemos que se acabará

pero claro no se trata de eso o nosotros entendemos que no se trata de eso y lo que le estamos planteando al gobierno vasco es algo muy simple oiga

buenos días bien tuvimos la ocasión todos los grupos de esta cámara de escuchar tanto en reuniones particulares como en la comisión de educación a los representantes de adostu a los que aprovecho para darles las bienvenida

asociación de docentes no universitarios jubilados de euskadi quienes nos contaron su preocupación y denunciaron los recortes y que pese a todo en todo momento han mostrado

y de alcanzar un acuerdo satisfactorio cosa que creo que es digno de resaltar esto comienza ya se ha contado un poco pero me quiero extender un poco en este tema comenzó en el año dos mil diez cuando el seis de julio de ese mismo año se firma un convenio regulador

que finalizaba el treinta y uno de diciembre del dos mil doce ese convenio

o más pertenecientes a muface jubilarse y cobrar una indemnización que entre otras cosas tenía el objetivo fundamental de favorecer el relevo generacional

por los servicios prestados en aquel momento en condiciones no precisamente fáciles para ello había una serie de requisitos que debían cumplimentar como llevar un determinado número de años trabajados o haber estado los últimos diez años

del país vasco la ley seis barra dos mil once de veintitrés de diciembre de presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi para dos mil doce

previsiones con el objetivo de la reducción del gasto público gran parte de las medidas son la consolidación en dos mil doce de las medidas de reducción salarial

de presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi para dos mil once donde refleja que quedan suspendidos en su aplicación para dos mil doce todos los acuerdos convenios o pactos cuya aplicación derivase incremento retributivo para el ejercicio dos mil doce y cierto es que esta medida se tomó en el gobierno

por tanto en aquel momento quedaron modificados los acuerdos reguladores o convenios colectivos de condiciones de trabajo del personal empleado de la administración pública general de la comunidad autónoma organismos autónomos y entes públicos de derecho privado así como de las sociedades públicas y fundaciones del sector público dependientes de aquella y también los consorcios del sector público y entre otras quedaron suspendidas las primas por jubilación

es cierto que esa medida azotó al profesorado de la enseñanza no universitaria que se iban a acoger a la jubilación voluntaria

pero es verdad que sin justificación aparente se ha ido alargando

para un colectivo que como se recordaba que es una especie de colectivo a extinguir puesto que estaba muy tasado a qué personas se refería y los que queden

son ya un colectivo de mucha menor importancia que el actualmente vigente que son dos mil seiscientas y pico personas posteriormente a esto vino el real decreto veinte barra dos mil doce de trece de julio

del mes de diciembre y la paga adicional del complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre con esta medida es verdad que se recaudó mucho dinero pero el problema siguió persistiendo hasta que se ha alargado en el tiempo y cado vez son más los jubilados que reivindican aquellos derechos

el gobierno vasco regula las bases para poner en marcha la jubilación parcial y el contrato de relevo en el colectivo docente que anteriormente se había suspendido y les había afectado al colectivo del que hoy tratamos esta colectivo es el que se ha visto más afectado

de tierra de nadie porque los anteriores pudieron cobrar y los que han venido después de esa suspensión se podrán acoger a la misma porque otros colectivos han podido cobrar las indemnizaciones por jubilación y han ido recuperando alguno de esos derechos con carácter preceptivo mi grupo quiere mostrar aquí

a que se dé una solución a este problema y entendemos que se puede dar porque ese derecho no está suprimido se ha recalcado también aquí está simplemente suspendido

recogiendo la esencia de la moción que el grupo parlamentario aralar presentó como ya se ha recordado en esta cámara el dos mil doce y por lo tanto

y que se acuerde en la mesa de negociación un planteamiento o un acuerdo calendario de pagos en función de las disposiciones de las disponibilidades presupuestarias actuales o de otros factores que puedan influirlo ese fue nuestro compromiso cuando

en la comisión de educación y lo queremos seguir manteniendo levantamiento de esa suspensión que actualmente sigue vigente en los actuales presupuestos y negociar un plan de pagos con la duración que se estime viable

eso debiera de corresponder al proceso de negociación porque entendemos la complejidad y las dificultades que tienen desde el punto de vista técnico y presupuestario pero nos parece que sería un paso importante para comenzar a desatascar

dos mil doce y quiero terminar agradeciendo la disponibilidad que ha tenido la asociación adostu el trabajo que han realizado

a todos los interlocutores a pesar de las circunstancias y creo que ese espíritu de alcanzar acuerdos tiene que tener también su correspondencia por parte

en concreto principalmente sobre una de las medidas contenidas en el ya citado decreto nueve barra dos mil doce

la medida relativa a las indemnizaciones por jubilación voluntaria nuestro grupo quiere expresar de ante mano al igual que lo hemos hecho cuando nos hemos reunido con ellos y ellas el reconocimiento y respeto hacia el colectivo de docentes de enseñanza pública no universitaria jubilados voluntariamente con especial consideración

hoy aquí presentes entendemos que igual que otros colectivos que prestan servicios públicos esenciales

no podemos cuestionar que se hayan podido sentir discriminados discriminadas al igual que se han podido sentir otros colectivos que han visto modificadas sus condiciones laborales

una actuación presidida por una visión de conjunto de la función pública vasca

son finitos y así nuestras propuestas las hacemos las hemos hecho y las hacemos siempre desde el realismo y la responsabilidad y dentro del marco legal y presupuestario que no es ajeno a ninguna administración tampoco a la que otros partidos

y por lo tanto entendemos que lo realista lo que se puede hacer con rigor es lo que recogemos en nuestra enmienda que es lo que en estos momentos entendemos que es asumible y dice el parlamento vasco

a que antes de finalizar la presente legislatura y previa negociación con la representación sindical suprima la prohibición relativa a la percepción de prestaciones económicas con motivo de la jubilación voluntaria

es decir solicitamos suprimir la prohibición de la percepción de prestaciones económicas con motivo de la jubilación voluntaria

una concreción temporal antes de que finalice la legislatura es un plazo máximo de dos años y es importante establecer un plazo porque todo desembolso importante pues requiere una planificación

como requisito la negociación previa negociación colectiva porque son en el ámbito de la negociación colectiva donde se priorizan los recursos y además estas indemnizaciones derivaban de un acuerdo sindical adoptado en mesas de negociación con lo cual su recuperación debe de venir en el seno de la misma

todo el sector público está sometido a la misma la que gobierna en el sector público gobernado por todos los partidos por lo tanto

es un paso adelante un paso adelante en un marco posible y realista en estos momentos que efectivamente no cierra otras vías como todos ustedes saben pero desde luego la solución no viene por una proposición no de ley

claro que estamos abiertos al diálogo escuchamos el gobierno escucha pero nos tenemos que mover dentro del marco presupuestario que este parlamento

se dote entonces efectivamente esta es una de las medidas no recuperadas pero se han restaurado otras muchas gracias al esfuerzo y el compromiso del gobierno priorizando y planificando con disponibilidad económica y dentro del marco legal y se ha optado cuando se han recuperado medidas se ha optado principalmente por medidas que han afectado al

empleados y empleadas públicas de la administración pública vasca y alguno de los ejemplos de estas medidas pues como saben se han retomado aportaciones a itzarri retomado los incrementos retributivos que antes habían estado prohibidos se ha recuperado la paga extra

y en concreto en las medidas contenidas en ese decreto nueve barra dos mil doce la situación no es la de dos mil doce

ha mejorado sustancialmente en concreto se ha recuperado el contrato relevo que usted señor hernández ha quedado en que se suspendió pues el contrato relevo

por unanimidad que establece un plan de jubilación parcial también se han recuperado los permisos horarios por razón de edad y se ha mejorado la regulación de los complementos

mejoras por lo tanto la situación inicial de ese decreto ha quedado mejorada es mejorable por supuesto pero está mejorada un decreto que como han expresado y no negamos nos opusimos

a la ley de presupuestos para dos mil doce que el mismo desarrolla

porque entendíamos que suponía un recorte social sin precedente y nos opusimos en cuanto a la forma y el fondo y así consta efectivamente

cuando había disponibilidad económica se prohibió y sin embargo luego después su recuperación pues requiere disponibilidad económica y mucha planificación y entendemos que la solución tampoco viene a través de la derogación de este decreto en primer lugar porque la situación no es la de dos mil doce y en segundo lugar y principalmente porque

desarrolla la ley de presupuestos citada y además

con lo cual la derogación de ese decreto tiene una eficacia jurídica nula porque la

y no del decreto como saben todos ustedes la única forma actual de modificar esta situación la única forma verdadera

de una proposición no de ley y esto es sabido por todos los firmantes de la enmienda transaccional

con la forma debida es lícito por supuesto que es lícito plantear la derogación de ese decreto por supuesto que es lícito

es que tiene un recorrido muy limitado porque la materialización práctica lleva aparejado un coste económico inabordable con el actual marco presupuestario con lo cual creemos que lo realista lo posible es lo recogido en nuestra enmienda y les invitamos a que

discutir por el lenguaje y cada uno utilizará el suyo

cuando se suspenden unos derechos y más allá cuando el levantamiento de la suspensión de esos derechos

pues es un recorte pero más allá

que la solución no va a venir de una proposición no de ley vale la solución no va a venir de una proposición no de ley ni de la nuestra ni de su enmienda porque la solución efectivamente la tiene que dar el gobierno pero el gobierno tendrá que dar una solución

el gobierno tendrá que dar una solución a este asunto es su responsabilidad pero tendrá que hacerlo escuchando al parlamento digo yo y las proposiciones no de ley

instar al gobierno vasco a que haga una serie de cosas y me parece que decir en el parlamento que las soluciones a los problemas que se planteen o que los grupos parlamentarios traen a la cámara no van a venir por las iniciativas parlamentarias del parlamento pues es devaluar absolutamente

en un teatro donde venimos a escenificar determinadas posiciones y ya está y a mí me parece que el parlamento debería ser otra cosa diferente que un simple teatro me parece que cuando los grupos

proponente traemos o traen iniciativas instando al gobierno

que creemos que son las que se tienen que hacer y en este momento hay una mayoría parlamentaria que ha acordado una transacción una mayoría parlamentaria además

tenemos al partido popular a eh bildu y a los partidos de mi coalición elkarrekin podemos efectivamente

que además vienen del colectivo afectado y que son justas y si el problema es de cantidades económicas

y sobre todo de pagar esas cantidades económicas perdidas en el tiempo no hay ningún problema señora larrauri

y en la iniciativa en la transacción que se presenta se habla de plan de plazos y por lo tanto esa cantidad de dinero

que se les ha recortado y que pretendemos que se acabe con ese recorte y que se devuelva se puede negociar y se puede negociar su devolución en plazos

y por lo tanto nosotros décimos que lo que ustedes plantean la enmienda que ustedes plantean

en primer lugar porque como decía antes no va a tener efectos retroactivos y por lo tanto esas cantidades nada nos garantiza que las vayan a recuperar y en segundo lugar porque nos parece que dejan las manos absolutamente abiertas al gobierno

en los presupuestos que hay otras prioridades y que no hay disponibilidad presupuestaria

que ya no estamos en la situación del año dos mil doce que estamos en situación mejor pero a la vez he escuchado que estamos de boca suya que estamos en un marco creo que ha dicho de ajuste económico no sé exactamente la expresión que ha utilizado

nosotros no estamos de acuerdo si ha aumentado la recaudación

del país por qué tenemos que mantener este recorte a un colectivo trabajador

a la que se ha llegado desde la oposición es la transacción es la iniciativa que debería aprobar hoy este parlamento

y por lo tanto lo que nos toca ahora al menos desde mi grupo parlamentario es repetir lo que he dicho antes pedirle al gobierno vasco que no devalúe

una cámara representativa y por lo tanto que no haga caso omiso a lo que la mayoría de las y los representantes de la ciudadanía hoy van a decidir en esta cámara que haga caso a lo que se va a aprobar

y se ponga a buscar la solución que esta hay planteada y sí con la negociación en la iniciativa nuestra se habla también de negociación con los afectados y también con los agentes sindicales con los que en este momento este gobierno no tiene precisamente la mejor

la verdad es que le oigo al señor pastor y parece que estamos de acuerdo con lo cual no entiendo cómo vamos a votar cosas cosas distintas y

y más si el gobierno no quiere también sabemos que no basta con derogar el decreto por eso también pedimos que se modifique la ley que da amparo a ese decreto

transaccionado también le voy a recordar que nosotros desde el principio les hemos planteado negociar y acordar

algo y parece que no es muy posible pero según la señora larrauri su enmienda pide

dice eso aunque yo no lo leo paramos ahora mismo y llegamos a un acuerdo y una transacción porque yo leo su

ustedes querían decir que se levante la suspensión y cuando haya disponibilidad presupuestaria

todo lo que se debe de antes no paramos ahora mismo pedimos un receso y firmamos una transacción si eso es lo que ustedes lo que yo le he entendido a usted en su discurso que ustedes están dispuesto a hacer lo que pasa es que alguien decía que las palabras son

tienen su importancia y más en un tema como este por qué porque curiosamente la enmienda del gobierno no dice que se levante que se suprima la suspensión dice que se suprima la prohibición

a la percepción de las indemnizaciones y desde cuándo había una prohibición dónde está esa prohibición por qué dice prohibición en vez de suspensión

se puede jugar para decir una cosa para decir otra o para decir la contraria

a lo largo de estos años en esta materia que nadie hablara de prohibición salvo en esta enmienda de los grupos que apoyan al gobierno y lo que tengo que entender es que están diciendo

de cobrar esas indemnizaciones cuando no es cierto

que me quedo con lo que usted nos ha dicho paramos ahora mismo llegamos a un acuerdo porque además los afectados son los mayores interesados en que el gobierno llegue a un acuerdo para solucionar su problema

yo les he escuchado a los dos atentamente y me ha parecido que coincidíamos pues paremos

lleguemos a un acuerdo si el planteamiento del gobierno es

la prohibición y abonar todo de golpe hombre nosotros planteábamos

de un calendario de plazos plurianual y el gobierno llegue a ese acuerdo porque mejor que el gobierno

pero si el planteamiento suyo es que se pague todo de golpe oiga

aunque no lo deduzco yo de su enmienda pero si de verdad lo que nos han dicho aquí ambos dos es lo que plantean

es que lleguemos a un acuerdo eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

bueno yo creo que aquí hemos partido todos de un análisis similar no

de oportunidad para abrir una negociación con el gobierno y creo que es la parte más importante de lo que hoy se ha tratado aquí porque por otra parte todos y cada uno de los representantes políticos que estamos en el parlamento todos ellos han manifestado su compresión y su apoyo a las reivindicaciones que planteaba

de jubilados ahora ya no de trabajadores por lo tanto si existe una voluntad política compartida desde el pnv a bildu pasando por podemos el pp y el partido socialista

puesto que se ha abierto hoy la oportunidad de abrir una negociación pues pongámonos a ello pero no esperemos al final de la legislatura para podernos a ello puesto que se va iniciar o debiera de hacerlo ya

pongámonos ya a establecer los cauces para hacer posible un acuerdo que dé solución a este problema es decir yo quiero entender que lo que hemos hecho aquí

de intentar dar un cauce de solución al problema

es así vamos a aprovechar ese cauce para darle contenido y hacerlo realidad y creo que nos debiéramos emplazar todos el gobierno también a empezar ya
ese cauce de negociación con este colectivo eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

diálogo y negociación por supuesto dentro del marco presupuestario que se dote este parlamento

ustedes dicen respetar al parlamento respeten ustedes al parlamento porque iniciativas parlamentarias hay de muchos tipos las proposiciones no de ley y las proposiciones de ley efectivamente para pedir esto que hoy quieren ustedes para modificar esto pues hace falta una proposición de ley y no una proposición no de ley nosotros respetamos absolutamente todas las iniciativas del parlamento y el gobierno también pero las cosas requieren forma y hablaba usted de mínimos y máximos el mínimo el mínimo en el que estamos todos es levantar la suspensión y el máximo el máximo es su enmienda transaccional

si no si no hay cesión en esos máximos es imposible a un acuerdo

que la única solución la única solución posible que está clarísimo que aquí tiene que haber retroactividad que no hay otra pues curiosamente

dictó una sentencia dando la razón al gobierno por un recurso de uno de los afectados decía el legislador competente en su caso el legislador competente este parlamento en su caso cuando decida

no está tan claro o no es la única opción que sea con efectos retroactivos y la negociación colectiva ustedes dicen claro algunos no es no en negociación colectiva mesas generales no porque no están otros no por supuesto la realidad

a veces se muestran ustedes como líderes de la negociación colectiva y sin embargo cuando no les interesa

no la nombran y una vez más creemos

para lanzar otro colectivo al gobierno por intereses partidistas me pesa que haya un colectivo que haya un colectivo detrás de ello pero desde luego hasta ahora no han traído ninguna iniciativa de la forma en el momento y en la forma se debe y eso es generar falsas expectativas el único instrumento que puede modificar esto como les he dicho es una ley y una ley presupuestaria y ustedes cuando se trajo aquí el proyecto

eh bildu y el partido popular no presentaron enmiendas tendrían otras prioridades decía usted señora ubera será cuestión de prioridad tendrían ustedes otras prioridades porque no lo recogieron como enmienda

hizo una enmienda al articulado que sin establecer el modo de ejecución sin decir de dónde quitar para poner aquí con lo cual

los presupuestos futuros en los presupuestos futuros del pp del partido popular bueno pero ustedes van a aprobar un presupuesto futuro de este gobierno van a aprobar solo esta parte qué harían una aprobación parcial del presupuesto van a aprobar ustedes un presupuesto de este gobierno

sorpresa o va a ser esa la única condición o no va a ser esa la condición no sabemos y en cuanto a levantar la suspensión

qué van hacer también van a aprobar la ley de presupuestos o solo van a ir aprobando unas modificaciones presupuestarias

el primer turno ha dicho señor hernández hipócrita hipócrita es esa esa postura la vuestra es hipócrita y el partido popular viene hoy de salvador de este colectivo pero bueno como ha dicho usted

colaboradores necesarios para quitar esto ustedes sabrían por qué decidieron quitarlo de aquí no sé si no les parecía en aquel momento mucho dinero les parecía que no era justo no lo sé pero fueron

han ido aprobando o dando el apoyo a los presupuestos que han seguido recogiendo esto por lo tanto

no echen balones fuera y además recientemente hace cuatro meses han aprobado ustedes un presupuesto que recogía esto y en cuanto a los efectos retroactivos pues esa desde luego es la postura que más llama la atención

y un compañero su grupo decía es una barbaridad le decía a bildu porque es un imposible es absolutamente ruin venir a proteger los derechos de los trabajadores y pedir algo que es materialmente imposible esa es la postura del partido popular hace dos semanas o sea cuando

doscientos millónes de euros doscientos millónes de euros solo en educación desde dos mil doce hasta dos mil diecisiete sin contar los ejercicios siguientes y ese es un cálculo estimativo que han hecho

desde el escaño por lo tanto sean responsables sean responsables

del instrumento adecuado de la ley de presupuestos para euskadi porque hasta ahora unos eh bildu y elkarrekin podemos no han tenido valor para aprobare ninguna ley de presupuestos y los otros el partido popular habrá tenido otras

y nosotras como siempre actuaremos con responsabilidad besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko larrauri

desde elkarrekin podemos impulsamos esta iniciativa con el objetivo de contribuir a ampliar la protección de derechos de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas esta iniciativa se registró hace unas semanas pero mi defensa y mis reflexiones me lo van a permitir

por lo que ha sucedido en los últimos días voy a tratar de ordenarme pero antes me gustaría decir alto y claro que yo si te creo yo si os creo

se acordó en el congreso un pacto de estado contra la violencia de género que contiene una batería de más de doscientos medidas para reforzar y mejorar la intervención orientada a la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres todas conocen la abstención de unidos podemos a este pacto

nunca las políticas que signifiquen un avance por mínimo que sea

pero también se quiso poner en evidencia que ese pacto era insuficiente y no estaba a la altura de este tiempo se quiso evidenciar que se tuvo la oportunidad de ampliar la mirada y la protección de derechos se tuvo la oportunidades actualizar las políticas de igualdad

la justificación de la abstención puede reunirse en cuatro puntos el primero las medidas no contenían garantías económicas temporales ni legislativas para ser ejecutadas la subcomisión acordó pedir un mínimo de compromiso económico de mil millónes

a repartir entre todas las administraciones del estado a cinco ejercicios económicos

de hecho han pasado doscientos diecisiete días desde que se aprobó el pacto y todavía hoy no se ha puesto en marcha segundo en este pacto no se incorporan políticas de igualdad que garanticen prevención para cambiar la sociedad machista en la que vivimos

tampoco se permitió la participación de mujeres y colectivos feministas como lo hacen en otros organismos como la onu o el consejo de europa y por último este pacto

contra la violencia de género sobre este último punto les comparto una reflexión para abrir el intercambio en esta ocasión o en próximas instancias en las que nos ocupemos

que merece una reflexión profunda y debates sosegados y responsables en el ámbito legislativo a nuestro parecer el desarrollo y desenlace de este caso

si desde el primer momento desde todas las instituciones que intervinieron habría tenido cobertura como un caso de violencia machista

porque sucede lo siguiente en la actualidad solo los casos de violencia ejercida por pareja o expareja están considerados como violencia de género en la ley orgánica uno barra dos mil cuatro

con profesionales formados en la materia aunque todavía queda muchísimo trabajo por hacer tal y como pudimos constatar en la visita que realizamos a los juzgados especializados de bilbao

con todo pueden ser más garantistas para las mujeres que otros juzgados multimateria que pueden carecer de la debida especialización porque no se les exige superar el marco conceptual y legislativo de la ley orgánica uno barra dos mil cuatro

que el pacto reconoce todas las manifestaciones de violencia machista

habría sido una oportunidad para desarrollar nuevas medidas y prevenir que se repitan

reconocidas de todas las mujeres como el caso de

en un marco normativo muy restrictivo por lo que no se analizó con la debida especialización en la materia o como el caso reciente conocido como juicio de la manada

de violencias por motivos de género y habría exigido para casos como los mencionados cobertura especializada en la materia a todos los niveles institucionales

porque hay mucho que analizar de forma sosegada en el reciente segundo caso pero de lo que no hay duda de lo que no tenemos dudas es que los argumentos del fallo carecen por completo de perspectiva de género están muy lejos de las recomendaciones del protocolo de estambul y a años

falta formación y especialización por supuesto es una reflexión en voz alta pero además de las necesarias declaraciones y adhesiones creemos que merece

responsable a todas y a todos los que tenemos encomendada la tarea en el ámbito legislativo volviendo al pacto de estado les decía

fue una forma de expresar el desacuerdo con la oportunidad perdida no obstante

como otra herramienta que puede ser útil para ampliar la protección de derechos y libertades además de alumbrar nuevas herramientas tenemos que sacarle chispas a lo que ya

y todo lo que se identifique como aportaciones positivas para ampliar protección de derechos son bienvenidas en diciembre se reunió la conferencia sectorial de igualdad siendo aprobado el pacto de estado para todas las comunidades autónomas se identificaron las veintiséis medidas para comenzar a implementar en dos mil dieciocho entre la batería de medidas propuestas en el pacto de estado puede haber algunas que ya se estén aplicando en euskadi

particularidades de la comunidad autónoma del país vasco y también

nuevas líneas de actuación en la materia el notable aumento de denuncias registradas en dos mil diecisiete

la jueza de vitoria aquella que preguntó si cerró bien las piernas o cerró toda la parte de los órganos femeninos o el fallo del juicio de la manada

y consternación pero además tienen que ser llamadas de atención

que nos lleven a impulsar mejoras legislativas y políticas para ello hay que utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance es imprescindible continuar trabajando realizar cambios redoblar esfuerzos y mejorar medidas para prevenir y dar una respuesta adecuada

crítico y de transición estamos ante una ventana de oportunidad tanto por lo que

que está consolidado fuerte y liderando una nueva agenda política que abarca todas las sectoriales como por el hecho de que se está

de ley sobre violencias machistas junto con la actualización de la ley de igualdad por todo ello consideramos que para sacar chispas a este pacto es necesario empezar por hacer un estudio de contraste entre

para después diseñar un plan de implementación en el marco competencial foral y local especialmente en todas aquellas medidas que contribuyan a ampliar mejorar o reforzar las políticas para la prevención detección temprana atención protección y reparación en situaciones de violencias machistas

pero sobre todo aprendamos de los errores no debemos perder oportunidades porque la realidad lo exige y porque estamos en un momento que reúne muchas condiciones

nos demos un debate sosegado y responsable en este parlamento tenemos preocupaciones compartidas tenemos compromiso tenemos voluntad

vasco proceso abierto de elaboración de un proyecto de ley

desde elkarrekin podemos seguiremos trabajando para que se produzca el debate abierto entre todas y todos y en todas las sectoriales desde un marco conceptual

porque es el único que pone de evidencia la profundidad y complejidad de esta vulneración sistemática de los derechos humanos seguiremos trabajando firme y con la mano tendida para aunar voluntades para que no se pierda absolutamente ninguna oportunidad de ampliar

la iniciativa que traemos hoy y el acuerdo al que hemos llegado es otra muestra más de ello lo celebramos y reconocemos el esfuerzo de todas por haber alcanzado este acuerdo

abesten du que somos la manada porque peleamos somos la manada porque nos tenemos y somos la manada porque nos cuidamos y yo quiero ser la institución que vaya a cuidar que vaya a estar al lado y cogida de la mano de todo ese movimiento

de género y hoy otra vez debatimos sobre una iniciativa traída a esta cámara por el grupo elkarrekin podemos podemos decir que en todas las iniciativas

prácticamente por unanimidad se han logrado avances avances para que los recursos públicos se gestionen de una forma más eficiente

de igualdad para que también se refuercen los programas de apoyo a las víctimas y también hoy sí que es cierto que como el acuerdo

de estado alcanzado en relación a las políticas a implementar en los sucesivos años en relación a la erradicación de la violencia de género no hemos introducido una previsión en este sentido pero como hay un acuerdo en esta cámara yo lo quiero recordar y sobre todo quiero recordarlo

este gobierno esperemos que esta vez sí cumpla los compromisos adquiridos ya no solo en el calendario legislativo sino el compromiso de la remisión de un proyecto de ley

es decir esperemos que esta vez el gobierno vasco tenga

cumplir sus compromisos los acuerdos del parlamento y sobre todo lo más importante que respete a este parlamento y que no

de mal gusto del último momento que desde luego evidencian

cámara y hacía los grupos que estamos representados en esta cámara por eso mi primera apelación al gobierno vasco remita al parlamento vasco el proyecto de ley que se ha comprometido a remitir y al que tantas veces ha hecho referencia el lehendakari y como también el lehendakari

intenciones constantes es diferenciar entre lo que es gobierno entre lo que es partido gobierno y parlamento pues que realmente

se aplique el cuento este gobierno y realmente remita las iniciativas que se ha comprometido a remitir en relación al pacto

prácticamente por todos los grupos en el congreso de los diputados se refuerzan todas las actuaciones que tienen que ver con la asistencia protección

en tres niveles el estatal el autonómico y el local y los ejes de actuación prioritarios son la sensibilización prevención

y también a los menores impulsar la formación de los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a las víctimas de violencia de género

y recomendaciones a las distintas administraciones públicas todos sabemos y como ha dicho bien y nos ha recordado la señora arana este pacto vincula a diferentes administraciones no solo a la administración del estado sino también a la administración autonómica

y en este sentido también tenemos que destacar la aportación van a tener las comunidades autónomas que va a ser mayor la financiación que van a obtener respeto al año dos mil diecisiete y en concreto van a tener una financiación

millónes de euros la diferencia con años anteriores en relación a la elaboración de estos presupuestos del dos mil dieciocho es obviamente que tenemos un escenario económico más favorable una tasa

social con un crecimiento acumulado o reiterado

se incrementa el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género derivado de ese compromiso del pacto

que como he dicho anteriormente no solo vincula la administración estatal sino también a otras administraciones se incrementa el presupuesto de la delegación del gobierno para la violencia de género en un veinticuatro coma sesenta y uno por ciento más de la previsión inicial del pacto de estado que era de un veinte por ciento

adecuación de espacios policiales donde se atiende a las víctimas y también

partidas especificas para los juzgados de violencia de la mujer unidades de valoración y asistencia jurídica gratuita en el departamento de empleo también va otra cuantía importante y también va en programas de actuaciones para la prevención integral de la violencia de género que se incrementan las dotaciones

un veinticuatro por ciento más que el dos mil diecisiete también figurando créditos para transferencias a las comunidades autónomas por importe de diez millónes de euros

sin fines de lucro otra cuestión también relevante es que se recoge una financiación para los dispositivos electrónicos el cumplimiento de las medidas de alejamiento campañas de sensibilización para prevenir distintas formas de violencia

que era otro de los puntos que se recogían en el pacto de estado contra la violencia de género

esta iniciativa y bueno nos alegramos de que

a pesar de que el grupo podemos al final se abstuvo en

del pacto de estado en el congreso de los diputados pues bueno haya considerado oportuno y yo creo que ha valorado finalmente de forma positiva el amplio

contra la violencia de género dentro de las competencias que tenemos autonómicas forales y locales y que se pueda elaborar un plan de implementación y que de ese análisis también se deriven

puntos que puedan ser incorporados en aspectos concretos como la prevención atención protección reparación y erradicación de estas violencias

que llegue cuando tenga que llegar y que el gobierno vasco cumpla sus compromisos y también y finalizo esperemos que el gobierno vasco también se de prisa

señora leixuri arrizabalaga bai es

señora arrizabalaga el gobierno tenía dos compromisos concretos adecuación de los espacios de justicia

también la habilitación de espacios específicos para maquinas

la adecuación de los espacios públicos va dirigido o va destinado a las víctimas y a los menores estas partidas consignadas en los presupuestos

para habilitar recursos para reforzar todas las medidas que están puestas en marcha y que algunas pues obviamente hay que reforzarlas y en ese sentido pues volvemos a instar al gobierno vasco a que cumpla los acuerdos presupuestarios y que pronto veamos la ejecución de esas dos partidas y que si realmente hacemos una apuesta

tenemos competencias y queremos además profundizar en nuestro autogobierno

muy clara y muy efectiva de profundizar en ese autogobierno es desde luego ejerciendo las competencias que tenemos y ejecutando las partidas presupuestarias

sí gracias presidenta bueno señora garrido aunque la ha nombrado solo a la portavoz del partido nacionalista vasco como sabe el partido socialista de euskadi también forma parte del gobierno y usted tiene un cuajo

esperemos que este gobierno esta vez sí cumpla los compromisos adquiridos esperemos que esta vez tenga a bien cumplir los acuerdos de este parlamento y que se utilizan triquiñuelas para no cumplirlos o sea lo dice el partido

ustedes amenazaron con la abstención hasta la última intervención de la portavoz del partido popular

para acabar votando a favor que yo me alegro creyendo que votaban a favor porque ustedes no iban a cumplir lo dejaron de cumplir al día siguiente de votarlo usted nos ha contado aquí una película que como toda la película es en función de los ojos que lo ven

y usted no ha contado la verdad de lo que ha pasado con el pacto de estado este pacto de estado se respalda con doscientos setenta y ocho votos a favor un resultado histórico

de las mayores lacras del país en una cosa del pasado era un clamor social

implicara a todas las instituciones en la sociedad aunque les guste a algunos olvidarlo

quien aprobó la ley orgánica integral contra la violencia de género fue un hito supuso una antes y un después en lo que se refiere a instrumentos legales

leyes iniciativas acciones públicas o privadas movilizaciones y presiones todo suma

y asesinadas por violencia machista probablemente podrían concluir ustedes conmigo

de la situación de desigualdad y discriminación que aun vive la mujer por el mero hecho de serlo

a pesar de haber nacido después de mucho trabajo con mucho optimismo el que había aquel día en el congreso de los diputados desde diferentes partidos políticos

sin ninguna negativa en menos de un año nos encontramos con un buen titular señora garrido pero

con los presupuestos generales del estado se frustran las expectativas de las víctimas que no de los partidos políticos faltan ciento veinte millónes de euros comprometidos usted nos puede hablar que efectivamente esto afecta al estado a las autonomías y a los ayuntamientos algunos poniendo de su dinero

como es el caso por ejemplo del ayuntamiento de irun de ahí

y la petición de comparecencia de la ministra del ramo para tratar el tema del incumplimiento solicitud registrada el pasado veintisiete de abril hoy es el primer día que se reúne la comisión desde el veinticuatro de julio que se aprobó este pacto un incumplimiento claro y sin ninguna duda

quinientos para las autonomías cuatrocientos para el gobierno y cien para los ayuntamientos este acuerdo se adopta cuando todavía no se había cerrado la aprobación de los presupuestos pero dijo la señora

textualmente la voluntad de gobierno es que haya presupuestos en los próximos meses de este año pero si no los hubiera

para incluir la partida de doscientos millónes palabras biensonantes

tienen acuerdo para sacar los presupuestos pero de los doscientos millónes nada desgraciadamente no han hecho falta muchos meses para poder llegar a una valoración negativa del cumplimiento del pacto

solo tres meses después el gobierno del partido popular seguía sin concretar la forma en que se ejecutarían las medidas que se aprobaron y presupuestariamente no se ha incrementado ninguna

es sobrecogedora la dimensión de la violencia machista y si ampliamos el concepto a lo que se entiende por violencia de género

el asunto que hoy nos ha traído aquí la señora arana es un tema de libertades derechos y de dignidad y de democracia

porque se dirige como hemos dicho a las mujeres por el mero hecho y voy terminando hablamos de un pacto de estado que tardó demasiado tiempo en llegar y demasiado poco tiempo en dejar de ser prioritario para el gobierno de españa los hechos debieran ser otros las partidas en los presupuestos además de ser anunciadas deberían aparecer en el proyecto la situación actual frustra en primer lugar a las víctimas sus familias y también a la mayoría de la sociedad que clama cada día más alto que la violencia de género el terrorismo machista debiera estar en la primera línea de la agenda política de cualquier gobierno porque la política debiera de ser el ejercicio que todos debiéramos de defender para poder conseguir lo que décimos que queremos lograr este pacto es político interinstitucional

que debiéramos escuchar la voz de la calle para llevar el clamor social a las instituciones hablamos de derechos y libertades denunciamos la vulneración de derechos humanos porque es cierto como he dicho que este pacto llegó tarde porque este pacto

pero no se puede consentir el vacio de recursos económicos bajo ninguna escusa

basada en cuatro ejes la prevención la seguridad la justicia y la reparación llegó el gobierno del partido popular y al primer eje lo cercenó de presupuesto

justicia o reparación hoy nos hemos dotado de un acuerdo de estado debemos velar por su cumplimiento por su dotación de recursos por dignificar aquello en lo que estamos trabajando por la sociedad en su conjunto pero sobre todo debiéramos hacerlo por las víctimas a las que no debiéramos de pagar con frustración desconfianza y mentiras yo

que cumpla los compromisos pero hombre señora garrido usted sabe perfectamente que este pacto nació de mucho trabajo de mucha necesidad de diálogo pero tendrá que reconocer que hay un incumplimiento y me parece que se dignifica la política diciendo la verdad

porqué se está dejando a las autonomías sin presupuesto porque no hay medidas concretas porque está muy bien

pero es que a este tipo de políticas como a todas o la dotamos de presupuestos o nunca será una realidad lo peor de todo

han conseguido lo que querían habrá presupuestos generales del estado y aunque la señora ministra dijo que pasara lo que pasará esos doscientos millónes iban a ser realidad no sé porqué me da que de esto nada y por cierto ayer salió una noticia en el periódico en el que el propio gobierno reconoce que falta esa relación de agresores que reinciden y por eso la falta de seguridad ante la violencia machista eso

lo tiene que reconocer el propio gobierno del señor rajoy a una pregunta de la portavoz socialista que obviamente no pudo decir otra cosa los números hablan lo que tenemos en las calles es no solo mujeres sino una sociedad harta de lo que está pasando y está muy bien que los gobiernos

firmemos proposiciones no de ley pero la política se lleva a cabo sobre todo con los presupuestos así que yo también espero que el gobierno cumpla pero el primero
el gobierno de españa porque estamos hablando de un pacto de estado nada más y muchas gracias eskerrik asko rojo andrea

viene a recoger más de doscientos medidas destinadas a erradicar una lacra que se ha cobrado la vida de novecientos dieciocho mujeres y niños y niñas desde el año dos mil tres

de este pacto nuestro grupo en el congreso de los diputados votó afirmativamente porque nos sentimos comprometidas firmemente en cualquier adaptación que sirva para dar un paso más en la erradicación de la violencia machista

la reunión daba cumplimiento a la proposición no de ley del congreso de los diputados que ya aprobó las doscientos catorce medidas que contiene el plan y que debía ser aprobado por la sectorial de igualdad en euskadi como en otras comunidades autónomas ya viene realizándose un trabajo estructurado fruto del cual se han venido implementando programas servicios y medidas diversas

muchas de las medidas propuestas que el pacto de estado propone ya están en marcha aunque entendemos importante señalar la coincidencia en el análisis de la problemática

entre las partes intervinientes el pacto se constituye como una herramienta que posibilita seguir avanzando

destacamos del pacto que haga referencia a poner el foco en el control de los maltratadores desde el punto de vista judicial policial y también social por ejemplo

gain como decía se trata de doscientos catorce medidas integradas tras escuchar a expertos y expertas que han comparecido en la subcomisión de igualdad

profundo y estructurado fruto del cual se han venido implementando diferentes programas servicios medidas y actuaciones orientadas a enfrentar la violencia contra las mujeres

como resultado de los trabajos de evaluaciones periódicas que se llevan a cabo y organizadas en diferentes grupos de trabajo y están también identificados los principales desafíos a futuro este pacto aun así ofrece a euskadi un avance cualitativo hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres

uno barra dos mil cuatro garantizará el derecho de ser reconocidos como víctimas los y las menores de edad

asegurará la formación de profesionales en intervención de reparación prevención y atención a víctimas ampliará recursos en el ámbito jurídico

entendemos que hay medidas complejas de ejecutar y que van a requerir de estudios de viabilidad

las diferencias territoriales son una realidad eso no lo podemos obviar y en este caso nuestro grupo pues cree que el reparto competencial es fundamental esta realidad tiene que ser respetada en euskadi venimos trabajando también desde hace tiempo en coordinar los departamentos de seguridad justicia trabajo salud educación departamentos todos ellos implicados en dar respuesta a la violencia contra las mujeres

la referencia el trabajo colaborativo en estándares de calidad de atención y se han identificado los desafíos y las cuestiones que abordar para seguir mejorando

en atención y prevención siempre es necesario garantizar que los hijos e hijas de las víctimas de violencia sean también reconocidas como tal es una de las medidas que a nosotras gratamente más nos ha llamado la atención es un tema que nos parece primordial y pues también recoger

integral ya recogía nuestra ley de igualdad del año dos mil cinco sí que tiene un concepto más amplio no solo de la violencia en el ámbito de la pareja o expareja y entendemos

de referencia en relación con las medidas

en ese pacto había unas veintiséis que estaban señaladas como urgentes por ejemplo las relacionadas con la asistencia y protección de los menores

otras medidas tendrán que esperar un poco más por ejemplo las relacionadas con prevención y sensibilización

gida plan hau eta hori ere azpimarratzekoa da gure ustetan en relación con las otras de las medidas que se deben implementar con urgencia

para los padres maltratadores o para los que estén dentro de un proceso penal o tengan orden de alejamiento

en cuanto a los protocolos de detección precoz en los centros sanitarios sí se pondrá en marcha una clave de seguimiento en las historias clínicas osasun

antzeman egin dira o por ejemplo en relación a establecer unidades de policía con formación específica en violencia de género que prestan atención todos los días del año

no me lo utilice usted como cortina de humo es que manda narices lo siento por el término pero que se debe aplicar

quien se debe aplicar el cuento son ustedes el gobierno de españa ha comprometido doscientos millónes de euros para dos mil dieciocho

la ministra y aun así no se ha llevado ninguna medida a cabo desde marzo que se aprobó y es que

y eso que asumimos que euskadi no entra dentro de ese sistema de financiación

son propios por tanto no me venga usted con cortinas de humo en relación con los compromisos adquiridos

la consejera que ya han empezados las obras en los juzgados de vitoria gasteiz

no me venga con que el gobierno vasco cumpla con sus acuerdos y competencias porque por supuesto que cumple y competencias cuantas más nos transfieran mejor porque más cumpliremos

efectivamente señora etxebarrieta cuatro mujeres menos desgraciadamente somos cuatro mujeres menos pero no vamos a dejar de luchar contra todas estas injusticias y vulneraciones de derechos humanos que sufrimos las mujeres solo por el hecho de serlo y debemos desde el rol que aquí nos ocupa estar a la altura de lo que la sociedad demanda de lo que el movimiento

demanda de lo que las mujeres nos están demandando lo que ha sucedido los últimos días además de indignación

sobre violencia sexual un debate que puede contribuir a analizar lo sucedido en la justicia y sobre todo a pensar en posibles soluciones

para promover la igualdad de género onu mujeres hizo unas declaraciones en su opinión el fallo supone un incumplimiento de las obligaciones claras de los estados de proteger los derechos de las mujeres lo cierto

ofrezca una definición sobre violación o abuso sexual sin embargo sí lo hace el convenio de estambul ratificado por buena parte de los estados miembros

sin consentimiento si no hay un sí no hay consentimiento solo nueve países sin embargo

y este parece que es uno de los problemas y otro de los problemas que

pese a ser modificadas tiene que haber operadores y operadoras de justicia preparadas para incorporar la perspectiva de género y hacer una correcta interpretación de la misma tenemos repito una gran oportunidad para seguir trabajando

también al gobierno vasco que ponga los recursos necesarios para erradicar las desigualdades y las violencias que sufrimos las mujeres

para que nunca más tengamos que rabiar ante una sentencia injusta tenemos que ser coherentes también cuando apoyamos gobiernos que poco o nada hacen por las violencias

cuando apoyamos presupuestos en euskadi que no son suficientes nosotras hicimos una propuesta no sé si se acordara para los presupuestos del dos mil dieciocho

en contra de una ampliación de presupuesto me gustaría nos gustaría a todas nosotras que todo lo que se está diciendo aquí en estos discursos

se traduzca realmente en presupuestos concretos y suficientes para erradicar las violencias machistas

a las calles nos toca a todas las que estamos aquí nos toca no apoyar presupuestos que no tengan perspectiva de género y aquí se están apoyando

y las violencias que sufren las mujeres seamos serias que aquí también hay presupuestos insuficientes se llaman el cero coma once por ciento eskerrik asko

bueno yo obviamente y este grupo se va a quedar con lo positivo con el avance y

con el avance que supone este acuerdo en relación a bueno pues políticas concretas y poder incorporar las medidas que puedan ser positivas y que puedan tener un encaje dentro de nuestro entramado interinstitucional que sin duda van a ser muchas pero

cuando era imposible absolutamente imposible era incrementar los recursos públicos destinados a las políticas sociales era cuando el gobierno del partido popular se encontró

cuando se encontró que por cada nuevo cotizante a la seguridad social se destruían tres empleos ahora se crean seis

pensiones o cuando se bajaron el sueldo de los funcionarios entonces sí que desde luego el gasto social no aumentaba todo lo contrario

el partido socialista tenía o tuvo el triste honor de ser el primer partido que congeló por primera vez las pensiones a los pensionistas y también bajada del sueldo a los funcionarios mire sin duda se podría hacer mayores esfuerzos hombre también me sorprende

hable de críticas en este caso al gobierno de españa cuando ustedes han tenido posibilidad en una negociación presupuestaria también de incorporar aquellas enmiendas

el de los pensionistas que está muy bien pero desde luego a las víctimas de violencia de género en los presupuestos generales del estado no han prestado la más mínima atención por lo tanto cada cual lo suyo y las cosas en su sitio yo creo que al partido nacionalista vasco pues también hay que decirle las cosas como son

dos mil once se ha aumentado la protección a las víctimas

administrativos y jurisdiccionales se han tipificado nuevos delitos en el código penal se ha aprobado el estatuto de víctima del delito con nuevos derechos para todas las víctimas se ha visibilizado por primera vez a los menores como víctimas con el acceso a servicios asistenciales

contra la mujer y se han arbitrado nuevos instrumentos de coordinación más medidas

para la financiación de planes de igualdad porque al final también la violencia de género y las violencias machistas están muy relacionadas con las cuestiones de igualdad se ha establecido un distintivo de igualdad en la empresa reconocimiento a empresas que destacan por sus políticas de igualdad

se ha incrementado el complemento de las pensiones por maternidad para las mujeres con dos hijos o más

un plan de igualdad de oportunidades que por cierto señora rojo dos mil catorce dos mil dieciséis para y violencia de género lleva la mayor consignación presupuestaria de toda la historia ciento veintisiete millónes de euros con ciento veinticuatro medidas desde luego zapatero no aprobó ningún plan

presupuestarias y también la aprobación de la estrategia nacional para la erradicación de la violencia sobre las mujeres y mire sí que es cierto ha sido un pequeño lapsus no citarle en la primera intervención porque usted forma parte usted el partido socialista de euskadi forma parte del gobierno vasco pero ya no es que forme parte del gobierno vasco que la consejera de trabajo porque lo voy a dejar en con la consejera de trabajo porque desde luego en lo que tiene que ver con compromisos adquiridos

pues ha cumplido muy poco yo le he puesto el ejemplo de dos partidas especificas destinadas a la lucha contra la violencia contra las mujeres la adecuación por cierto señora arrizabalaga no era de los juzgados de vitoria era de los juzgados de bilbao

ningún euro de esa partida lo mismo que la disposición de maquinas para con abastecimiento para las personas especialmente

de violencia de género en esos espacios por lo tanto desde luego aquí esfuerzo por parte del gobierno vasco nada en todo caso destacar el esfuerzo y de la consejera del ramo que por cierto es del partido socialista el esfuerzo la sensibilidad y el trabajo de todos los trabajadores públicos eso que hay que destacar

del viernes pasado en donde este gobierno tuvo pues la desfachatez política

de incumplir el compromiso de remitir un proyecto de ley que tenía comprometido en el calendario legislativo

que en reiteradas ocasiones el lehendakari se ha comprometido en esta tribuna y en

asistimos al bochornoso espectáculo de que dos grupos que apoyan al gobierno por cierto

edo gaiarekin jarraitu nahi duzu esperemos que este gobierno cumpla y en este caso como

periodo de sesiones pues esta vez se remita un proyecto de ley y no se remita una proposición de ley que por cierto

bukatu zaizu denbora sí señora presidenta me parece un ejercicio absolutamente partidista el que acaba de hacer usted denbora bukatu zaizu euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

me parecería mucho más inteligente y más honesto cuando alguien hace algo mal o deja de hacer algo es reconocerlo que tampoco pasa nada

ha querido atacar al partido socialista metiéndose con la consejera que lleva la responsabilidad de justicia usted el partido popular y dice todo lo malo que ha hecho esta consejera en materia de justicia el mismo partido

votó en contra de que hubiera juzgados especializados en violencia de género que por cierto es el mismo partido que ahora pide uno más

juzgado especializado todo coherencia y además le voy a decir más pero es que además ustedes

el partido popular en el senado bloquea que las víctimas de violencia de género tengan asistencia jurídica gratuita hombre señora garrido es que qué decir la realidad es una y los votos que cada uno damos en las instituciones son los que son

antes de pretender meterse con una consejera que creo que está haciendo lo que tiene que hacer y además que usted aplaude cuando dice el tema de los juzgados especializados

y entonces ustedes que son muy aficionados para todo les vale el señor zapatero

que si no hubiera existido lo hubieran inventado y entonces para esto también la culpa

y me parece que usted ha hecho una equiparación hombre poco acertada hablar del tema de la violencia machista

uniendo esto a las políticas sociales es que las mujeres no somos política social

de libertades y de ciudadanía es la diferencia entre lo que unos entendemos

y lo que entiende un partido conservador como es el partido popular no se lo creen señora garrido y firman pactos para no cumplirlos

un duro y le voy a decir más por estos gestos que me está haciendo cuando le miro y le voy a decir el partido socialista habrá cometido muchos errores

ha reconocido errores de mi partido la diferencia entre usted y yo

faltaría más y menos mal que nos equivocamos y le diré cuando el partido socialista pone sobre la mesa un derecho para la mujer ya llegará el partido popular para dar diez pasos para atrás y ustedes presentaron el recurso a la ley de igualdad

y pusieron un recurso a la ley del matrimonio homosexual que hablaba de libertades y de derechos en el dos mil doce y ustedes en este reforma laboral tan buenísima que según usted ha dado tan buenísimos resultados

usted sabe perfectamente que restaron las medidas de conciliación a las mujeres

un tren que se llamó el tren de la libertad el año dos mil catorce

tuvo que retirar un proyecto de reforma de ley del aborto que también era un derecho para la mujer por tanto

señora garrido una y el partido popular habrá hecho cosas que yo no digo que no

pero lo que no le voy a permitir es que se meta con mí partido en lo que tiene que ver con la política de igualdad hacia las mujeres perdone que le diga

haría cosas mal pero creo que en lo que tiene que ver con derechos y políticas de igualdad vamos no le llegan ustedes ya no digo ni al tobillo ni por debajo

pero desde luego la señora ministra esa que dijo que aunque el pnv no aprobará los presupuestos generales del estado ya modificaría el que tenia

mintiendo porque no se lo creen porque creen que la política de igualdad es de segunda porque siguen creyendo que es una maría porque mientras unos creamos un ministerio otros han hecho una dirección de la que nunca habla el señor ministro señora garrido

y contarnos aquí una serie de mentiras intentar disfrazar la realidad

y tumbarle todos y cada uno de las cosas que usted ha dicho siendo mentira y por último le diré aquella ley que fue un hito

que por cierto ustedes votaron también a favor que salió con unanimidad decían que era una operación de marketing pues para ser una operación de marketing anda que tomaron ustedes nota del tema

y por concluir en el primer turno se ha hablado del tema de la sentencia de la manada que decía la señora arana comenzaba diciendo yo te creo yo también

y porque quiero que haya políticas para que eso no vuelva a suceder hablaba de una sarta de barbaridades que desde luego yo no comparto el pacto de estado

tenía una medida formación de jueces en tema de igualdad

desgraciadamente tendremos que volver a hablar de temas como estos porque tenemos una sociedad con una gran lacra y una asignatura pendiente pero desde luego un partido conservador y de derechas lecciones ni media

eskerrik asko mahaiburu andrea señora garrido el tema de los pensionistas es un acuerdo previo

de todas formas le quería volver a repetir si no le ha quedado claro en el primer punto o si no lo sabía no me está atendiendo pero bueno se lo digo el sistema de financiación no nos afecta aquí en euskadi

la financiación es propia de acuerdo por tanto entendemos que no hay que entrar a tratar ese tipo de temas en relación

de control la consejera de trabajo y justicia acabamos de ver la transcripción léaselo señora garrido dijo diez actuaciones en el palacio de justicia de vitoria

y en relación con el proyecto de ley para la erradicación

contra las mujeres está contemplado en el calendario legislativo entonces le vuelvo a repetir

este es un gobierno serio y este es un gobierno serio que cumple y usted lo sabe pero usted sabía que el punto de hoy iba a ser muy dura para usted y para su grupo y usted lo que ha pensado es bueno ante sí sí un buen ataque es una buena defensa pero

es que con los datos que le ha aportado la señora rojo ustedes se sonrojen hoy aquí porque realmente en cuanto a políticas de igualdad

como para sacar pecho y la verdad es que sinceramente creo que esto hoy no tocaba esto hoy no tocaba lo ha querido sacar usted aquí vuelvo a repetir porque

o algo tenían que alguna culpa tendría y han venido ustedes aquí a atacar para defenderse una pena

frackinga ez dela egin behar ezta eta gero y esto es un poco el colmo o sea otra de las cosas que anula el constitucional es

no ya un precepto de la ley sino una definición de la ley cuando décimos en la ley que son recursos no convencionales los hidratos de metano enterrados en el mar viene el constitucional y dice ay pícaros

los recursos no convencionales os metéis en el mar y así rompéis el principio de territorialidad bueno en cualquier caso una parte de la ley

lortutako adostasunarekin lortutako erdibidekoarekin eta noski babestuko dugu celebramos el consenso que se va a producir

de la proposición inicial de eh bildu creemos que va en la línea del espíritu que defendía la ley seis barra dos mil quince

y que tenía como propósito proteger nuestro medioambiente de los perjuicios que podía provocar el fracking

se amplía hoy al consenso claro y amplio de que la extracción de gas mediante la técnica del fracking es perjudicial es nociva y es mala mala para el medioambiente mala para las personas es mala porque utiliza cientos de sustancias químicas nocivas

y provoca que salgan fluidos tóxicos de ese subsuelo fluidos tóxicos que vienen en forma de contaminación del aire en forma de gases

con la utilización del carbón y es nociva y es mala porque provoca la contaminación de las aguas provoca la contaminación de las aguas con metano

nos satisface celebramos que exista un consenso

a esa contaminación a ese perjuicio y en torno a la necesidad de proteger nuestros acuíferos nuestra agua potable y la salud de las personas que viven en el territorio

beste atal batzutan es necesario es necesario que este consenso que tenemos hoy en día sobre el fracking se amplíe a otras cuestiones relativas a la política energética no estaría mal que tuviéramos consenso hoy también en que fue necesario hubiera sido necesario mayor espíritu crítico hace siete años

es necesario hubiera sido necesario un mayor consenso en torno al nefasto papel que tuvo la sociedad vasca hidrocarburos

en la promoción de una técnica que a todas luces era perjudicial y que aun así la promocionaron

les paró los pies es necesario hubiera sido necesario un consenso en torno a la miopía que mantuvo y que sigue manteniendo el ente vasco de la energía

y nos gustaría que esos consensos fueran posibles y nos gustaría que fuesemos capaces de alcanzar esos consensos y nuestro grupo seguirá avanzando en ese sentido en el consenso de que lo que necesitamos no es seguir apostando por energías caducas como el gas lo obtengamos con el fracking

con las prospecciones convencionales sino que el futuro está en el ahorro y en la eficiencia en la promoción de las energías renovables

este consenso de hoy que es importante no servirá para nada gracias eskerrik asko becerra jauna euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

yo creo que podríamos decir que ya es un tema zanjado en euskadi yo creo que ya nadie lo defiende ni en términos económicos porque todo

observando la historia sobre todo en estados unidos que de ahí se podía hacer poco negocio y socialmente se sigue defendiendo en la calle lo mismo que se defendió durante el transito hasta hacia esa ley que nos ha explicado

otero y políticamente a día de hoy en ese momento no hubo ningún voto en contra o abstenciones pero hoy esta iniciativa sale por unanimidad que yo creo que denota

parlamentarios en esta cámara defendemos en lo que tiene que ver con la fractura hidráulica por tanto yo creo que el posicionamiento de todos los partidos políticos

después de mucho trabajo y mucho debate siempre supimos que

y lo que estábamos esperando es si la ley se anulaba totalmente como ha ocurrido en otras comunidades autónomas o como ha ocurrido en el caso de euskadi que solamente se han anulado unos

que tuvimos durante todo el proceso de trabajo hasta acabar en la votación de esa ley la diferencia que hay hoy respeto a otros debates en lo que tiene que ver con este tema es la sentencia del tribunal constitucional ante ese recurso de inconstitucionalidad este recurso era contra los artículos dos tres cinco y seis

y es ahí donde yo creo que nos debiéramos de centrar hoy por un lado como he dicho es importante reconocer que la sentencia no invalida toda la ley

plasmación de los artículos concretos en la ley y aprendimos

sobre todo yo creo que de la catalana es necesario destacar la validez constitucional que el tribunal ha otorgado al artículo cinco de la ley vasca del fracking habida cuenta que la previsión que ahí se contiene

que el mapa de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos declare de vulnerabilidad media alta o muy alta

la ley de aguas queda redactado completado y validado en los siguientes términos queda prohibida toda actividad o uso susceptible de provocar directa o indirectamente la contaminación o degradación de las aguas continentales superficiales y subterráneas

y en particular el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales

o de cualquier naturaleza salvo autorización administrativa previa y expresa de ura

exigida por tanto quedando el artículo la ley de aguas vasca así

del fracking por tanto queda prohibido el uso de esta técnica para la explotación de hidrocarburos en aquellos espacios clasificados como de riesgo de vulnerabilidad

siendo esto así ese mapa adquiere la categoría de herramienta de referencia para desde la planificación territorial y urbanística garantizar la protección de acuíferos y evitar la localización de determinadas actividades contaminantes

al artículo veintinueve punto uno de la ley de aguas supone el reconocimiento expreso de la capacidad

en el entorno de los acuíferos con mayor riesgo de vulnerabilidad existentes en el ámbito de euskadi prohibiendo como décimos

esto resulta especialmente relevante en álava que es donde los proyectos más importantes estaban que era en la comunidad autónoma de álava muy cerca del municipio de vitoria donde se ubican acuíferos calificados con riesgo en más de un cincuenta por ciento

la redacción completa de ese artículo una vez declarada constitucional por el tribunal

desde el órgano que tiene atribuidas las competencias en materia de aguas pueda abordarse de manera objetiva

de treinta de junio de medidas adicionales del fracking creo que esa ley fue un éxito desde el principio porque supuso que los partidos políticos tuviéramos

en lo que la comunidad autónoma necesitaba creo que nos hicimos

de las propuestas que estaban en la calle de aquella iniciativa legislativa popular

a los hechos nos podemos remitir hoy euskadi tiene una ley a diferencia de otras comunidades autónomas el tema de los acuíferos era una preocupación que existía en euskadi como digo había

y efectivamente con esta proposición no de ley queda claro que la preocupación es compartida y que el gobierno vasco está dispuesto a hacer ese mapa a actualizarlo teniendo en cuenta
las afecciones subterráneas nada más y muchas gracias eskerrik asko rojo

el gobierno renuncia a la práctica del fracking porque a día de hoy no hay garantías de que esta técnica sea respetuosa con el medioambiente

ez zuen zergatik gehiago gehitu behar por lo tanto como ya apuntaba

ya está superado la decisión está tomada y el criterio es claro no en euskadi no habrá fracking porque es la voluntad mayoritaria de esta sociedad y la voluntad política firme de este gobierno y de este parlamento

el compromiso es firme como digo y además tenemos la suerte de que los permisos para la exploración están en manos públicas por lo tanto seamos consecuentes y no nos dediquemos a airear debates y fantasmas del pasado ha llegado el momento de enfrentarnos al futuro

un acuerdo de país en materia energética y que entre todos y todas seamos capaces de responder al reto que la transición energética nos plantea

establecida en dos mil dieciséis a través de la estrategia energética de euskadi dos mil treinta se fundamenta en un proceso de transición hacia el uso mayoritario de fuentes renovables

debemos desvincularnos definitivamente de los combustibles fósiles y llegar a emisiones netas cero de gases de efecto invernadero a lo largo de este siglo con las energías renovables como único suministro energético

para su empleo mayoritario debemos garantizar el abastecimiento energético de nuestra sociedad y de nuestra industria con los recursos existentes tanto muy pocos como los que importamos y de los cuales somos casi totalmente dependientes en este contexto nuestra obligación y responsabilidad es conocer con todo el detalle posible los recursos energéticos de que dispone nuestro territorio para poder tomar decisiones en materia de política energética

de toda la población vasca en esta materia dentro del abanico de fuentes de energía que actualmente consumimos el gas natural es la fuente energética que mejor cumple estos requisitos

en este sentido la estrategia

prevé un aumento del abastecimiento energético por gas natural de siete puntos porcentuales entre dos mil quince y dos mil treinta del treinta y cinco por ciento al cuarenta y dos por ciento

y el carbón se mantendría en un residual uno por ciento en conclusión nos guste o no va a aumentar el consumo de gas natural y la dependencia del exterior por lo que encontrar y en consecuencia producir recursos propios de gas sería muy positivo esa es nuestra opinión la de mi grupo

hacia un nuevo modelo de menor y mucho más eficiente consumo energético

aprobar la ley de eficiencia energética antes de que concluya este periodo de sesiones

la ley de movilidad sostenible que en breve llegará a esta cámara debemos desarrollar la energía eólica terrestre la solar fotovoltaica la hidroeléctrica la producción mediante biomasa

contribuir al desarrollo de otras tecnologías como la eólica marina o la solar termoeléctrica no todas tienen ni mucho menos el mismo nivel de madurez y de su desarrollo dependerá en gran medida que el futuro vaya en una u otra dirección

debe mantenerse en su decisión de caminar firmemente hacia la sostenibilidad del sistema energético en sus aspectos medioambientales determinados por su impacto en el clima en los niveles de contaminación y en la disponibilidad de recursos limitados en lo sociales y económicos

que exige la actuación anticipada y permanente para sortear y minimizar

hoy hemos conseguido un acuerdo entre todos y todas como suele decirse todos hemos dejado pelos en la gatera o hemos tenido que tragarnos algún sapo en aras al consenso

como persona que aspira a la soberanía plena de este país no me produce ninguna satisfacción más bien todo lo contrario el aceptar en el mismo párrafo la denuncia

cercenan nuestra capacidad de legislar en materias que nos corresponden y a la vez pedir al gobierno que denunció esa misma ley que prohíba esta técnica por encima de nuestras competencias

y más de finales espero que sigamos en esta dinámica

porque insisto para encauzar la transición energética como se merece

necesitamos un acuerdo de país en materia energética estos son los retos seguir a vueltas con el fracking es tan actual como seguir discutiendo
sobre don carlos o el petróleo eskerrik asko legebiltzar buru andrea eskerrik asko grajales jauna

gracias señora presidenta consejeros señorías desde el grupo popular tanto

y la fractura hidráulica o fracking como también en la aprobación de la ley

y competencias que desde nuestra posición como comunidad autónoma podemos aplicar con el fin de incorporar un nivel más alto de protección

especialmente para aquellas zonas de especial protección está claro que el espíritu de la ley fue y es evitar la actividad de fracking en la comunidad autónoma vasca dado que

puede tener para el medio natural son muy importantes máxime cuando

los distintos permisos para exploración y posterior explotación son tan próximos a zonas muy sensibles nos referimos por ejemplo al acuífero de subijana reserva de agua de álava y de nuestros vecinos vizcaínos acuífero de subijana y afloramiento

a los que se asocian humedales naturales y en general numerosos

a nivel europeo por la directiva hábitat está claro

la resolución del tribunal constitucional nos ha limitado algunos aspectos de la ley pero yo me he fijado mucho

por la que se solicita informe ambiental informe evaluación de impacto ambiental ordinaria para el proyecto de sondeo exploratorio convencional del pozo armentia dos

y en las características de potencial impacto se dice no es el fracking es una exploración convencional

y reconocido por el promotor es la afección de unas seiscientos metros cuadrados de interés comunitario seis mil doscientos diez situado en el extremo norte de la parcela por su parte la instalación de la conducción para abastecimiento de agua es susceptible de afectar

del río zadorra cuestión que no se puede descartar en este momento

de información más detallada para pronunciarse del mismo modo tampoco se ha estudiado la posible incidencia de la presencia de la conducción sobre el itinerario verde

senda de pastoreo por lo que no se puede descartar su afección además dice de los potenciales impactos que la perforación de sondeo conlleva principalmente

de un plan de gestión que el promotor ha pospuesto a fases siguientes la posible afección indirecta de la zona del río zadorra

así como la potencial afección del acuífero de las calizas

estamos hablando de una exploración convencional quiero decir con esto que nuestra oposición

y la manera que queríamos proteger era más que justificada

desde la dirección de medio ambiente se dice todas estas afecciones que puede tener porque dice más dice que

consultados sobre el riesgo radiológico del proyecto el consejo de seguridad nuclear ha advertido que durante el periodo de pruebas de larga duración

un impacto radiológico significativo para los trabajadores y el medio ambiente y eso que estamos hablando de una exploración convencional

de los ripios a extraer también dice que a pesar de que el promotor argumente que la perforación de armentia uno

su preocupación por el posible impacto sobre el mismo por ello consideran necesario ampliar la información al respecto para garantizar que la posible afección

relevantes habida cuenta de su importancia medio ambiental y su valor estratégico como recurso de agua de calidad señorías cuando

a favor de este proyecto de ley creo que los argumentos eran válidos y siguen válidos y señorías tenemos permisos de exploración convencional encima de la mesa y estos son los posibles impactos por lo tanto

no se acaba el proyecto de ley que hemos aprobado

el espíritu para la exploración no habrá no convencional pero si hay convencional y eso tenemos que seguir controlándolo y seguir atentos y señor grajales yo le quiero hacer una pregunta

leído una cita el gobierno renuncia al fracking porque no hay garantías

es una buena cita pero es el final de un proceso y cómo empieza ese proceso el proceso

unas empresas buscan un negocio y esas empresas convencen a un gobierno

de que ese negocio es bueno los gobiernos promueven ese negocio la sociedad civil le encuentra inconvenientes problemas al negocio que normalmente suelen ser problemas para todos y todas

y finalmente la sociedad civil o bien convence al gobierno o si el gobierno se pone tonto acaba ocupando el gobierno y finalmente el gobierno prohíbe el negocio

cierto pero qué ha sucedido en los seis o siete años que hemos perdido hasta llegar a esa frase y qué papel ha jugado

o ha sido reactivo claramente reactivo a día de hoy incluso ya renunciamos al fracking hay consenso en torno al fracking pero ustedes siguen

siguen diciendo hay que conocer los recursos que tenemos hay que conocer los recursos que tenemos si el fracking y el gas convencional son dos caras de la misma moneda

no renovable convencional que no es rentable fíjese le voy a enseñar dos noticias que no tienen ni diez días

cuatro días después noticia el gasto del gobierno vasco para explotar el pozo de gas en la rioja se dispara a los treinta millónes ese es el nuevo debate que tenemos ya no hablamos del fracking ahora hablamos de este otro debate

y coincido con usted en que hace falta un acuerdo de país en materia energética coincido completamente pero están ustedes el gobierno en una encrucijada tienen que decidir

no es rentable el uso de gas no quiere decir eso que no sea necesario utilizar gas de forma transitoria pero invertir en investigar el gas no nos lleva a nada no nos lleva a nada y no vamos a ser nuestro grupo quienes

hace seis o siete años estábamos fuera con la pancarta que ahora

sala y todos ustedes se ponen detrás de la pancarta porque es lo que sucede pero no es esa la cuestión la cuestión es que aquí

son la ciudadanía que a día de hoy va a gastar más o menos en el consumo energético y esa es la cuestión entonces nuestro grupo ya lo he dicho desde el principio está abierto a llegar a un consenso

pero si se trata de seguir buscando gas que aunque exista el recurso no va a ser rentable de explotar pues evidentemente ahí nuestro grupo no estará

usted ha hablado de dos gobiernos como si fuese uno solo y yo tampoco voy a hablar de vencedores y vencidos pero le diré

en aquellas manifestaciones en la que usted estaba detrás de la pancarta con el señor otero

es decir no creo que elkarrekin podemos encabezase desde todas las alcaldías que tiene en territorio alavés

digamos de la plataforma ciudadana los ayuntamientos hicieron su papel no creo que ustedes en aquel momento

mire a ver si hay mucha gente es probable que el partido nacionalista esté entre los que van detrás de la pancarta y para terminar

señora lópez de ocariz no sé qué me ha querido preguntar con ser arte y parte en cualquier caso le diré

y parte es denostar el fracking aquí y votarlo a favor en madrid

y parte es votar a favor de una ley aquí y denunciarla ante el tribunal constitucional en madrid eso es ser arte y parte y si no me ha entendido se lo diré en castizo

en misa y replicando vamos a decirlo bien

si no me ha entendido lo siento ya se lo explicará alguien no se preocupe si como le decía para una exploración convencional

estamos viendo que desde los servicios técnicos nos dicen

y le he relatado alguno pero hay más porque es una serie de peticiones que se hace desde los servicios de medioambiente por lo tanto cómo no vamos a estar en contra del fracking y cómo no nos va a preocupar ustedes tardaron

ahora se ponen la medalla tardaron en reaccionar pero es que señorías aquí tenemos un grave problema se ha hecho mención vemos algo que es anormal tenemos una empresa de hidrocarburos pública para explorar

lo que sí sabemos y tenemos datos es de lo que gastamos que llevamos enterrados millónes de euros millónes

y cuál es el resultado nada y va a seguir pues mire

seguir en su actividad fracaso tras fracaso enterrando millónes de euros nosotros creemos que ha llegado el momento

gracias señora presidenta señor consejero consejeros señorías presento esta moción consecuencia de la interpelación que presentábamos al señor consejero el pasado trece de abril referente al abastecimiento

el señor consejero nos instaba al grupo popular a ser parte de la solución

le recojo el guante y en ello estoy presentando esta moción que trata de buscar la mejor solución a una cuestión muy antigua como es el proyecto

en pleno siglo veintiuno primer cuarto del siglo avanzado y hablamos de infraestructuras

para la población que se viene demorando más de treinta años parece mentira pero esto es así hablamos de algo tan básico

en condiciones dignas el aspecto social pero es que cuando hablamos de despoblación rural de los pocos ayuntamientos que está creciendo en población y tiene demanda de crecer en población es el ayuntamiento de zuia y urkabustaiz es de las pocas zonas del medio rural de álava

y sin embargo no se puede aumentar más están las normas el plan de estos ayuntamientos paralizado porque no hay abastecimiento de agua

pero también hablamos de la situación que se genera cada verano

que se quedan literalmente secos y nos preguntamos dónde está ura dónde está la inspección de aguas el pilar fundamental de la gestión del dominio público tal y como dice en la propia web de ura

al resto de la organización ura las presiones a las que se encuentra sometido el dominio público también debe tomar medidas en campo encaminadas a reducir los impactos sobre las masas de agua y comprobar el cumplimiento de las condiciones que se establecen en las autorizaciones

la inspección de aguas debe hacer un seguimiento del aprovechamiento de las aguas y del mantenimiento de los cauces qué ha hecho ura ante la situación prolongada en el tiempo es decir desde que ura existe

en el río bayas sus afluentes y los ríos del entorno de momento mirar para otro lado le decía al señor consejero

pero sí es el responsable del departamento que debe ejecutar esta infraestructura y como bien decía en la interpelación

y ejecutar una solución que por un lado de respuesta a las necesidades de abastecimiento

y por otro se proteja y se mejore el estado ecológico de las masas de agua afectadas entorno natural de gran valor la parte medioambiental del proyecto en la interpelación se dio cuenta del largo periplo que la posible solución al abastecimiento del valle de zuia urkabustaiz ha tenido por las distintas administraciones y cómo una vez acordado el proyecto de abastecimiento al alto bayas

y como consecuencia de la crisis económica se paraliza

esta era urgente ya hace tiempo y estamos ya en el dos mil dieciocho y este proyecto técnicamente finalizado y los trámites administrativos y ambientales están listos para ser activados en el momento que se acuerde iniciar las obras y ahí estamos

con un proyecto a punto de ser empezar a ejecutar y el señor consejero hacía referencia al acuerdo marco de julio del dos mil diecisiete de me decía si no lo conocía sí lo conozco señor consejero y me deprime porque es que yo he conocido

para las mismas obras que se acordó en el dos mil cuatro que luego se hizo otro acuerdo en el dos mil ocho que se incorporaron algunas obras y que estamos

demorando diez años las obras que se acordaron en el dos mil cuatro

yo no le hago responsable le digo porque se lo toma como una cosa personal pero es que es su departamento a quién quiere que le hable

porque en definitiva estoy recordando a todo el gobierno que tiene pendiente la ejecución de esta infraestructura no es a usted personalmente es al gobierno vasco que es el responsable

nos en la interpelación se ve claramente pues aquí ha habido

paralizado a punto de poder ser ejecutado y con la falta de disponibilidad económica y es que claro en ese acuerdo marco que ustedes han firmado dos mil diecisiete dos mil veintisiete el abastecimiento de

o del alto bayas como se denomina más correctamente es responsabilidad de ejecución del gobierno vasco por lo tanto creo que usted debe implicarse más y además lo han dejado

señor consejero creo que cuando hablamos de abastecimiento

potable para los ciudadanos creo que tenemos que poner prioridades en la ejecución de las obras y esta es una prioridad básica fundamental y como le decía antes uno de los pocos ayuntamientos que tiene demanda para crecer y no puede crecer porque no tiene abastecimiento asegurado

y además no podemos crecer en aquellos puntos donde hay demanda de crecimiento creo que es importante

y que se haga cuanto antes y por eso nosotros presentamos la moción una moción en la que instábamos al gobierno primero que junto con la diputación lleguen a un acuerdo de adecuar

al periodo más apropiado que entendemos es el primer periodo

por qué porque le digo que es prioritario el abastecimiento y me resulta llamativo que lo hayan demorado al segundo periodo llamativo muy llamativo

lógicamente partidas presupuestarias para afrontar esta infraestructura yo si me toca colaborar o compartir al grupo popular

dificultad en contribuir en la manera que podamos pero

ustedes tienen que tener voluntad y yo no le he visto la voluntad por lo tanto señor consejero creo que es hora de que tomemos esto en serio porque yo vista la enmienda que ha presentado los grupos del gobierno

esta enmienda que ustedes han presentado vale para cualquier infraestructura me da igual

o sea dicen el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que continúe y si es posible incremente la disponibilidad económica para las inversiones a realizar en abastecimiento y saneamiento en el territorio alavés

sino no sabemos de qué habla ustedes no hablan aquí del abastecimiento del zuia hablan de inversiones futuras o sea quiero decir que ustedes no le dan importancia usted cree que a los habitantes de zuia

y la consideran que ustedes han pensado en ellos pues yo creo que no y eso es muy triste porque estamos hablando como le digo de abastecimiento

el saneamiento de la obras a realizar en el territorio alavés en colaboración con la diputación foral de álava y las entidades locales

prevista en el resto de los territorios y aplicando para ello criterios de coste beneficio entendiendo estos dos últimos conceptos en términos sociales económicos y ambientales pues esto es nuevo verdad

vamos a aportar en todas las inversiones ahora un informe de coste beneficio eso incorporan ustedes en los proyectos que están desarrollando

informes criterios de coste beneficio un informe hombre

cuando estamos hablando de abastecimiento para la población cómo qué parámetro se pone

el saneamiento por ejemplo es el mismo les parece igual no han tenido en cuenta para nada

falta de agua potable para consumo en determinados periodos estivales realmente señor consejero

moción se han presentado una enmienda del grupo podemos y hemos llegado a una enmienda de transacción en la que

modifiquen el acuerdo marco para la financiación y ejecución de infraestructuras hidráulicas en el territorio histórico de álava con el fin de introducir el abastecimiento del alto bayas en el horizonte dos mil dieciséis dos mil veintiuno obra asumida por la agencia vasca del agua

y favorecer el mantenimiento de los caudales ecológicos de los ríos afectados

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a reflejar las consignaciones presupuestarias oportunas para afrontar las obras de abastecimiento

del acuerdo marco para la financiación y ejecución de infraestructuras hidráulicas en el territorio histórico de álava también décimos instamos al gobierno vasco a iniciar con carácter urgente los trámites administrativos y ambientales que quedan pendientes del proyecto de abastecimiento del alto bayas

de infraestructuras hidráulicas en el territorio histórico de álava

instamos al gobierno vasco a que a través de la agencia vasca del agua ura garantice el mantenimiento del caudal ecológico necesario tanto en el río bayas como en todos sus arroyos y afluentes con el fin de mejorar la calidad ecológica de los cauces y los ecosistemas de ribera en el punto quinto décimos que el parlamento vasco insta al gobierno vasco

en la elaboración de sendas ordenanzas municipales dirigidas a promover el consumo responsable de agua potable en sus municipios en particular

hídrica señorías esta es la moción que hemos llegado porque el gobierno bueno

no ha podido aproximarse ni ha podido ofrecer un texto de aproximación una pena realmente una pena porque creo que no corresponde

estamos hablando de infraestructuras que están muy retrasadas en el tiempo y que además se deben de priorizar y creemos que los abastecimientos

debía ser una urgencia básica y por lo tanto señorías nosotros insistimos a que reconsideren esta situación y que no andemos chalaneando por el ayuntamiento de zuia y de urkabustaiz no

pues va otro y dice no yo creo que va a empezar el veinticuatro no igual

ya vale están aburridos están hartos llevan treinta años escuchando promesas también el grupo socialista el partido socialista en el dos mil doce cuando estaba gobernando en el gobierno del señor lópez

a empezar la obra en el dos mil quince en plenas elecciones municipales también se iba a empezar la obra oiga eso ya está muy

promesas incumplidas muy hartos por lo tanto yo me gustaría que reconsideren esta situación y que voten a favor de esta iniciativa y que

impedimento para poder colaborar en los presupuestos en la partida

pues señorías organicen los recursos y prioricen eskerrik asko lópez de ocariz andrea

lortu dugu eta noski gure taldeak babestuko du vamos a exigir al gobierno que cumpla sus compromisos vamos a exigir que cumpla sus compromisos porque el abastecimiento de agua potable es

de forma especial a su calidad de vida diaria y este derecho básico no puede estar sujeto

y se vaya hasta dos mil veintisiete para arreglarlo veinte años no son de recibo y es verdad que este problema se agravó debido a un crecimiento urbanístico inadecuado en el caso de zuia

se promovieron quinientos viviendas se promovió un incremento de población del más del treinta por ciento sin que hubiera

y ahí también una vez más el gobierno actuó de una forma irresponsable

se metió más población sin que hubiera recursos para ello porque y aquí hay que decirlo los recursos hídricos el agua potable es un recurso escaso nos parece que es inagotable y más viviendo en euskadi pero no es una recurso escaso

exige una gestión responsable y por eso en nuestra enmienda hacíamos referencia a dos cuestiones importantes la primera la necesidad

de forma responsable de usar el agua de forma responsable sobre todo en verano de hacer un consumo responsable de ello y proponíamos y proponemos y nos alegra de que el grupo popular haya admitido esa cuestión dentro de la enmienda que se hagan ordenanzas municipales en esos municipios para hacer un consumo responsable del agua

para utilizar de forma responsable el agua en las piscinas y en otros usos superfluos porque el agua es escasa pero además proponíamos y seguiremos proponiendo que se haga un desarrollo urbanístico sostenible en aquellos municipios que tengan problemas de recursos como en este caso

de que va a haber agua potable para todos y todas y esto es una apelación que hay que hacer a todas las instituciones implicadas en esta cuestión porque es muy fácil aprobar planes urbanísticos es muy fácil aprobar normas subsidiarias que luego van a traer problemas

pero si las necesidades básicas de las personas son importantes no lo es menos las necesidades básicas de los ecosistemas donde viven esas personas y aquí tengo que hacer referencia

porque se respeta el caudal del río principal pero se secan durante el verano

el agua potable y sin embargo no nos damos cuenta de que si incumplimos la cuestión de los caudales ecológicos si incumplimos las necesidades básicas que necesitan los ecosistemas tarde o temprano la gente que vive ahí va a sufrir esas consecuencias también porque su calidad de vida se va a ver mermada más de una vez he defendido

que la calidad del medioambiente y la calidad de vida de las personas van indefectiblemente unidas tener una buena calidad de vida si el ecosistema donde van a vivir esas personas no tiene una buena calidad también bukatzeko esan behar dut noski

en nuestra proposición en nuestra transaccional que el gobierno cumpla sus compromisos y que utilicemos que empecemos a crear una cultura del uso responsable del agua porque siempre va a ir en beneficio de la calidad de vida de las personas y en beneficio de los lugares donde habiten esas personas

me había preparado otra intervención pero bueno no voy a poner aquí a repetir lo que dijo el señor arriola

cuál era la posición del gobierno que es lo que se está haciendo de dónde viene la situación en qué momento empieza

y cuáles son los planes de gobierno respecto a este tema y por tanto no les voy a volver a aburrir contándoles lo mismo aunque fuera de otra manera

ha sido imposible el acuerdo porque estábamos muy lejos de llegar a él porque el texto era muy diferente el que presentábamos los partidos que apoyamos al gobierno de lo que presentaba usted y lo que acabo negociando con el señor becerra con el apoyo del señor otero

pero usted sabe cuál era lo que usted proponía usted sabe qué es lo que proponía el gobierno usted sabe quién estaba dispuesto y quién no estaba dispuesto a negociar y lo sabe usted perfectamente entonces si no quiere que se acabe contando las cosas tal y como fueron pues no tiente porque sabe que encima yo

por tanto no ha habido acuerdo porque no ha sido posible dejémoslo ahí pero no diga que era muy complicado y que el gobierno se acercó porque usted sabe igual que yo que eso no es cierto

pero bueno ahí segunda posibilidad para explicar realmente cómo sucedieron las cosas bien primer punto segundo punto

que el señor arriola como consejero de en este caso de responsable de ura

va a la página web de la diputación de álava

y hay un acuerdo marco ese que usted denosta tanto que usted sabe perfectamente todo lo que ha costado llegar a un acuerdo

y entonces nos encontramos con que esta obra efectivamente está planificada

y dos mil veintisiete con un presupuesto que llega casi a los dieciocho millónes de euros y usted dice

claro si hay que pagarla y además usted es una parlamentaria que trae muchas veces a esta cámara las infraestructuras hidráulicas necesarias en la provincia de álava y las trae como reclamo porque las considera necesarias imprescindibles

pero cuando vamos a ese acuerdo marco vemos el abastecimiento de sobrón

saneamiento del alto nervión por cierto que parece que algo tiene que decir el ministerio

saneamiento de manzanos saneamiento de lagran solución al saneamiento y depuración de legutiano solución al saneamiento y depuración de artziniega y tenemos dividido entre las dos fases

y el resultado final esta es la parte que le afecta ura pero es que luego en ese acuerdo marco

vuelve a hablar del abastecimiento de sobrón la conexión de las captaciones de amurrio izore y mejora de abastecimiento la red primaria de larrinbe berganza y berganzagoiti colectores de valdegovia saneamiento de gopegi ondategi solución de saneamiento y depuración de alegria

marco de ura es un total de casi setenta y cuatro millónes de euros la primera fase supera los veinticinco y la segunda fase supera los cuarenta y ocho

esto es un compromiso con una planificación en años concretos

de las dos instituciones implicadas porque tiene claro que hay que hacerlo y además el señor arriola le dijo que lo iba a hacer pero es que hay que pagarlo y usted dice se habla de prioridades usted nos planteaba es que hay priorizar es que esto es necesario

dieciocho millónes de euros de estas obras que le he dicho cuál quitamos

que también eran reclamados y necesarios en la zona de zuia

por tanto no podemos decir aquí alegremente que hay una falta de compromiso que no existe voluntad y luego se habla así muy gratuitamente del tema de los presupuestos

eso una y luego ya igual nos sentamos y llegamos a un acuerdo o no

es muy complicado llegar a un acuerdo para este tema para el pacto de estado de violencia de género o para lo que ustedes quieran pero no es justo

no se quiso sentar de forma legítima con sus motivos pero no quiso hacerlo y señora lópez de ocariz aquí tenemos el lado contrario ustedes sí negociaron los presupuestos y no estaba esta partida presupuestaria de dieciocho millónes de euros oye que ojalá que estén para el próximo ejercicio presupuestario

por tanto creo que decían a cada uno lo suyo y tal

el gobierno este gobierno en el departamento del señor arriola marcó una planificación hizo un orden de prioridades entendió qué es lo que tenía que hacer y marcó los ejercicios presupuestarios

que también era reclamada por ser imprescindible y algunos parlamentarios pudimos visitarla la legislatura pasada como es el tema de busturialdea que es

y que efectivamente se lleva una parte del presupuesto de ura muy importante y que se necesita liberar para a seguir actualizando las cosas pero existe compromiso existe planificación

no se puede decir que hay que reconsiderar el tema es que no hay que reconsiderar nada

y lo tiene marcado por tanto quiero decir que a veces venimos aquí a decir cosas gratuitas las páginas web porque estamos en

a meses a tiempos partidas presupuestarias lo que es abastecimiento lo que es saneamiento quién está si es la diputación si es el gobierno vasco si tiene que pagar algo los ayuntamientos si no tienen que hacerlo por tanto

considero importante que no haya que faltar a la verdad y de ahí

venía la enmienda que los grupos que apoyan al gobierno planteaba que se continúe que se incremente si es posible de acuerdo a la planificación

oye si el partido popular o elkarrekin podemos son tan generosos que nos ponen los dieciocho millónes de euros

se replanteará cómo hacerlo y luego por concluir decir pues cómo están hoy las cosas cómo está hoy este tema técnicamente finalizado

es verdad que también a esto afectó la crisis económica como le he dicho ura recientemente concluyó la edad y la red de colectores de zuia por cierto no gratis siete millónes de euros superados por esta obra este proyecto como usted dice viene de muy atrás

ya concluidos pero con esa crisis que influyó en los plazos y en el cumplimiento por tanto digo que este gobierno no pretende demorar la ejecución de esa infraestructura porque también la reconoce necesaria e imprescindible para la zona como acabamos de decir ura

de hecho en el acuerdo marco para la financiación y ejecución de infraestructuras hidráulicas en el territorio histórico de álava que se suscribió

se recogen estas obras de abastecimiento como compromiso estas y otras que ya le he dicho pero además también podemos hacer la comparativa con las otras dos provincias que también tienen reclamaciones y obras que consideran imprescindibles sus diputaciones

en los planes de trabajo del gobierno vasco y concluyo con unas palabras textuales que dijo el señor arriola en su intervención el pasado pleno de control

teniendo en cuenta entre otros factores la disposición de recursos económicos la entidad del problema a solventar el balance coste beneficio en términos sociales económicos y ambientales

de lo que ha parecido aquí después de escuchar sus intervenciones les preocupa y nos preocupa piden planificación y la planificación está hecha pero en esto creo que no debieran echar balones fuera donde no existen

y como no es responsable ha entendido que debe hacerlo pero a su tiempo y con su presupuesto nada más muchas gracias eskerrik asko

muy original en este inicio de intervención porque voy a subrayar cuál es el principio rector de las políticas hidráulicas del gobierno para el regocijo de la

y es la más lógica de todas y es que la obra hidráulica cuesta muchísimo es una inversión muy fuerte

desde su legítima discrecionalidad se hace siempre priorizando el criterio como se ha comentado anteriormente de coste beneficio y esta lógica hay que tenerla interiorizada

invertida el estado de bienestar cada día cuesta más y el dinero que se le puede dedicar a la obra pública es una evidentemente no para hacer

en dos mil catorce he podido revisionar el debate que hubo en esta cámara acerca de este mismo tema

debatió justamente lo que estamos debatiendo hoy y en aquel debate se coló una trama secundaria un asunto derivado de este que era

y en ella se comentaba exactamente con los mismos argumentos lo desastroso de los

a dos mil diecisiete el consejero aquí presente

que ha costado y está costando su ejecución una gran cantidad de dinero el sistema recolector está adjudicado al menos

el tramo principal y por tanto es un sistema que funciona pero hay que hacerlo de forma

la oposición va a unir sus votos al parecer para modificar el orden de prioridades que se establecía en el acuerdo marco que el gobierno vasco firmó en julio del año pasado

le emplazaría a los tres grupos de la oposición a que nos digan a que nos enriquecieran con sus pareceres técnicos

es decir cuál de los proyectos contemplados en la primera etapa dos mil diecisiete dos mil veintiuno quitamos e incluimos en la segunda porque esto y es un argumento

damborenea esto son habas contadas y son las gallinas que entran por las que salen por tanto

es casi necesaria pero sin pasarse sailburuak interpelazioan

horrela dio el estado de conservación del rio bayas es superior a la mayoría de los ríos de la cav así lo demuestran por ejemplos los robledales de roble pedunculado existentes en los bosques de la rivera del municipio la calidad del agua es aceptable y luego menciona
isilduko gara mesedez en un listado la incidencias de actividades y riesgos en el medio natural

sesenta y ocho el segundo es la presión recreativa que hay en el gorbea

que van y ejercen una presión sobre el medio natural el tercero es el abandono de las actividades agrarias tradicionales el cuarto son los aprovechamientos forestales y el quinto debe ser que debido a los ataque de lobos el ganado no sube al monte y no lo limpia no

sí se menciona el problema de la toma del agua y sí se menciona esa falta de caudal que existe en verano que es real nadie lo puedo negar porque es algo es una precisión técnica

los mayores problemas se deben a la captación que se realiza al rio y que le afecta de forma importante en verano

se mejorará la calidad del rio como ha dicho la señora rojo

esa edar ya está ejecutada y en marcha los estados ecológico y físico del agua desde el dos mil catorce hasta dos mil ocho que es la fecha en la cual está hecha este informe dos mil cuatro bueno bi mila bost bueno bi mila sei bueno bi mila zazpi bueno estos son la calidad físico química y en general

necesaria porque sí es cierto que esa población está limitada tiene limitado su crecimiento a pesar de que posiblemente a posteriori en caso de que

repensar también el modelo existente en la zona pero en general

está calendarizada el gobierno ha dicho y no tenemos

hemen eskatzen dela cambiar el orden de prioridades cosa que yo no he visto

que se incluya una urgencia o sea que se cambie el acuerdo marco para que se incluya la urgencia

y nos dice también que qué proyecto quitamos ninguno nosotros no estamos hablando de quitar ningún proyecto o por lo menos nosotros lo que estamos diciendo es que aquí tenemos un problema que viene de lejos

que podemos hablar de los primeros informes de los años ochenta pero desde luego que ha tenido varios capítulos y a alguno haré referencia

y que es mayor que el problema concreto del abastecimiento

arrazoia ematen dizut legítima discrecionalidad

no no porque este gobierno termina su moción en el dos mil veinte y de la misma manera que ustedes están diciendo que esto es un problema que viene de lejos y que claro no pueden cargarse ustedes todo el muerto del problema del abastecimiento

pues va a pasar lo mismo con el siguiente gobierno no sabemos quién va a estar

ustedes han hecho lo que hacen los malos futbolistas patadón para adelante

porque este es un problema que viene de lejos y este es un problema que la

el dos mil catorce trajo aquí a este parlamento y efectivamente ustedes en ese momento lo tenían muy claro lo tenían muy claro votaron a favor sin ninguna duda

que ese instaba con carácter urgente a que el gobierno vasco licite las obras del proyecto constructivo del abastecimiento de zuia urkabustaiz

del proyecto constructivo del abastecimiento de zuia urkabustaiz ustedes lo tenían claro

hubiera presupuestos para esto algo a lo que evidentemente

porque partíamos otra vez de esos presupuestos recortados como digo enormemente sobre lo que venía de años anteriores

no son lo suficientemente no sé si numerosos o importantes como para que el gobierno vasco el anterior y ahora este considere

que va a costar diecisiete millónes de euros con lo cual se van

con la diputación foral de álava en la que evidentemente calendarizan y priorizan y lo dejan como secundario como algo que va a venir probablemente después de que ustedes no estén en el gobierno es decir

porque usted me puede decir que no sé cómo decir o sea este año no se puede

pueden ustedes hablar de que se van a aumentar los presupuestos y que evidentemente ustedes le dan una importancia prioritaria al abastecimiento de agua de zuia y urkabustaiz y por consiguiente

antes de que se termine la legislatura las partidas presupuestarias comprometidas pero cuando ustedes lo parten en dos y dividen por un lado dos mil dieciséis dos mil veintiuno y después dos mil veintiuno dos mil veintisiete y enmarcan este obra en ese segundo periodo están haciendo insisto

y ya veremos porque eso es al final a lo que se están resignando legislatura

esan duzue baita ere que eso que lo tienen marcado

y que hay una planificación pero es que de lo que están hartos y hartas

es precisamente de planificaciones se ha dicho ya hay un acuerdo marco de dos mil cuatro incumplido modificación del dos mil ocho incumplido y en el último acuerdo marco que se firma el año pasado

los compromisos adquiridos por las partes no se han completado en su totalidad evidentemente

y esto lo que hace es eternizar el problema no asignar recursos y ya veremos se les está diciendo a los habitantes

que tal vez según el plan director de

que tal vez podemos estar hablando de dos mil veinticuatro cuando a un ayuntamiento le dices

que viene ya prometida y casi enfilada desde el año dos mil siete y en el año dos mil diecisiete le dices

es que no la vas a hacer eso es lo que le estás diciendo es que ya veremos es que ya veremos

estamos hablando de inversiones importantes no es el chocolate del loro creo que fue la expresión que utilizó

va para cuando ya no tenemos o podemos no tener responsabilidades del gobierno con lo cual

hacemos como que tenemos una inversión importante que no es el chocolate del loro con cincuenta millónes de euros comprometidos por parte del gobierno vasco pero en este primer periodo de dos mil dieciséis dos mil diecisiete hasta el veintiuno ponemos dieciocho

que es a la que nos podemos comprometer pero no solo eso sino que además de dejar la mayor parte de la inversión para un futuro o futurible que ya veremos décimos

que para entonces habrá terminado el plan estatal actual y habrá una nueva planificación hidrológica con lo cual es posible que a las obras que tenemos sin terminar se nos añadan

con lo cual volveremos a tener ese mismo problema porque se nos habrán amontonado los problemas si terminamos las obras que tenemos que terminar en el

que va precisamente al año dos mil veintiuno que es con lo que ustedes sí están jugando con un paso más firme pues seguramente no tendríamos que dejar todas las obras
a la especulación y a los devenires de posibles futuros arreglos y en esas estamos eskerrik asko otero jauna

señora rojo aquí hay hemeroteca para todos le han mencionado el acuerdo que

ustedes en el dos mil catorce en el dos mil quince apoyaban al gobierno y metían partidas presupuestarias metieron ustedes alguna para el abastecimiento de zuia el grupo popular sí puso una enmienda y fue rechazada por ustedes por lo tanto señora rojo hay que repasar todo pero es que es más lo dije el otro día en la interpelación en dos mil catorce

decía un procurador en juntas generales de álava del grupo socialista decir que el proyecto está en estos momentos redactado

en muy breve tiempo saldrá a información pública la financiación también se puede decir que es a cargo de ura y que en el año dos mil quince hay ocho millónes de euros

dos mil veinte con diez millónes de euros hay un proyecto y está trazado es un acuerdo del gobierno vasco a través de ura

cuando le he dicho que es que estamos haciendo chalaneo permanente

y ahora están haciendo lo mismo paseándose por

presupuesto mire lo tenemos muy fácil ha sacado antes el señor becerra el recorte de prensa pero lo tengo aquí también

mire si cerramos esa solucionamos todas las infraestructuras hidráulicas pendientes

sabe qué pasa por qué estamos en esta situación porque en los años

pero no fue prioritario nunca para el pnv y tampoco para el partido socialista

importante estuvieron dilatando y hoy no hay una planificación hay una dilatación de la planificación que había ya en el dos mil cuatro por lo tanto no aburran a los ciudadanos lo quieren hacer si o no lo pueden hacer porque qué pasa qué si ponemos ahora dieciocho millónes en el presupuesto

entonces que pasa que el acuerdo marco nos la saltamos nos da podemos solo es cuestión de eso pues lo tiene muy fácil muy fácil señorías no hay voluntad y prueba de ello es la enmienda que ustedes hacen

ni la citan porque la moción la interpelación y la moción es concreta concreta a una obra y ustedes se evaden en el tuntún

esta situación de verdad que es que es llamativo no tienen argumentos y el presupuesto ustedes

y ahora lo que hacen es pasarlo a dos mil veintisiete

ya se cumple el acuerdo marco señorías yo creo que aquí hay muy poca voluntad para afrontar esto como se merece que ya

la palabra de este debate es prioridad y yo no voy a poder ser más claro

pero lo que es evidente es que aquí en el caso de zuia urkabustaiz no hay prioridad

arruabarrena que la oposición va a cambiar la prioridad en absoluto no tenemos capacidad de cambiar la prioridad si no gobernamos ya nos tocará ya nos tocará pero de momento no podemos

que el abastecimiento de agua potable es un derecho básico es un derecho básico básico los derechos básicos no son inaplazables sino son prorrogables

efectivamente la priorización la hace siempre el gobierno siempre hace la priorización y hace los anuncios cuando un gobierno anuncia que va a hacer una obra tiene que tener partida presupuestaria y si no que no lo anuncie el señor arriola lleva sufriendo esto pues toda la legislatura anuncios convenios acuerdos que le han suscritos otros antes y que ahora él no puede cumplir porque no tienen dinero porque eran acuerdos vacíos

solo hay una institución y cuando un partido compromete la palabra de una institución

que le vamos acabar llamando con todos los respetos el señor ojala porque en cada comparecencia dice ojala tuviera yo ojala pudiera y le han dejado la hucha vacía

lo que no es de recibo señora rojo es que si ustedes como partido socialista han llegado a un acuerdo en el que le han dado tres carteras del gobierno de irrelevancia de ninguna relevancia política y encima sin presupuesto le digan a la oposición

si ustedes no son capaces de negociar con el partido dominante tener ese dinero pues no no sigan en el gobierno no sigan en el gobierno digan

ustedes sabrán por qué lo que no puede ser es que

es porque ustedes en el gobierno no tienen fuerza para demandar como ha dicho la señora lópez de ocariz que el dinero que empleamos que enterramos en el gas

para sacar agua potable por ejemplo y este acuerdo

es un acuerdo vacío más señor arriola señora roja porque

de este acuerdo dice en cada una de las actuaciones recogidas en el acuerdo marco

en el que se detallaran las tareas por parte de cada una de las instituciones así como sus compromisos en la ejecución de las actuaciones es decir

un acuerdo marco vacío que está diferido hacía la siguiente legislatura donde posiblemente ustedes mismos saben que no van a seguir gobernando

y lo que la oposición venimos denunciando y hoy lo denunciamos una vez más gracias eskerrik asko becerra jauna

cierta obsesión de momento aquí está gobernando el partido socialista señor becerra y usted es la oposición

usted tiene proyecto de país proyecto de presupuestos proyecto de todo incluso es portavoz de medio ambiente y le parece irrelevante políticamente

es que creo que usted se ha equivocado y además le considero una persona responsable

usted no puede decir que las tres carteras que lleva el partido socialista son irrelevantes no lo puede decir

a los consejeros del partido socialista por qué es irrelevante la negociación colectiva mire en el pleno que viene es irrelevante la justicia gratuita para las mujeres maltratadas es irrelevante la ley del fracking es irrelevante los acuíferos es irrelevante el comercio local que están pidiendo en todas las ciudades y municipios de euskadi no no perdone usted ha dicho tres carteras de irrelevancia política punto eso es lo que ha dicho pero podemos

titulares luego rasca y no hay nada porque aquí está muy bien eso de

que malo el partido popular pero pedro sánchez a casa y así nos va y ahora resulta que tanto bildu como podemos deben tener una bola de cristal

va a estar usted pregunto pregunto porque oye hasta hace dos años no querían ni oír hablar de poltronas pero en fin uno llega aquí y parece que la realidad cambia es que no es lo mismo hablar fuera que hablar dentro no es lo mismo los titulares que quedan para el diario de sesiones que a la hora de hacer política de verdad y ustedes les guste o no faltan a la verdad

sí quién ha arreglado el tema de los colectores y del abastecimiento bildu

o el departamento que dirige el señor arriola pregunto porque a ver si vamos a estar viviendo en dos euskadis diferentes que creo que vivimos en dos euskadis diferentes para muchos temas que creo

y usted dice como saben que no van a estar volvemos a la bola de aramis fuster pues claro proponen esto para el dos mil veintiuno me quiere decir señor otero

tiene cuatro años desde que se planifica hasta que se puede inaugurar una dígame una mira le iba a decir un ejemplo mejor no lo voy a decir porque luego todo queda

y tiene un proyecto de país no está pensando en los cuatro años que estamos en el gobierno

cambió el cuento y a casa que no es así que aquí se hace una planificación y tú haces un diagnóstico de la situación con las infraestructuras hidráulicas y ves a quién le afecta quién tiene que pagar y quién está implicado en el proyecto y llegas a la consejería el señor arriola

y dice estas treinta cosas hay que hacer orden de prioridades partidas presupuestarias necesarias porque claro también podemos proponer

parece que no va a ser y que si lo quiere traer tendremos que ver cuánto cuesta

y sobre todo faltar a la verdad y es lo que ustedes hacen y les guste o no está obra está planificada

y se va a hacer y coge lo que él considera que tiene que hacer dentro del departamento y dice

les he dicho yo cuánto dinero cuesta en que año se va a hacer y es más el gobierno proponía incluir en la enmienda comenzar en dos mil veintiuno

porque no es verdad que no se quería poner un plazo es que no es verdad por tanto somos conocedores de la situación y somos conocedores de qué es lo que hay que hacer

es que ustedes parece que pasaban por ahí en todo esto es que el partido socialista y el pnv que son los que han gobernado años de bonanza me quiere decir una legislatura que el partido socialista haya estado en años de bonanza que igual tenemos que retrotraernos a ramón jáuregui porque vamos

fue el lehendakari de euskadi todos sabemos cómo estaba la situación económica hoy que está el partido socialista gobernando en coalición con el pnv sabemos cómo está la situación económica y por cierto que cuando gobernaba el señor lópez ustedes apoyaban los presupuestos no pasaban por allí condicionaban metían partidas presupuestarias y por cierto

no estaba y me dice usted a mí no es que la hemeroteca si yo defiendo lo que

que hay que hacerlo pero que hay que poder pagarlo y que no hay que mentir y no hay que decirles a los ciudadanos lo que quieren oír

podemos llegar a un acuerdo si quiere firmo la enmienda pero no

y dije hay otros que firmarían lo que no se cumple pero yo no voy a faltar a la verdad señora lópez de ocariz porque no se puede cambiar un acuerdo marco porque sí

y sino no se cambia y este acuerdo se firmó en julio y estamos a primeros de mayo y usted quiere ya cepillárselo que esto no es así por tanto nos preocupa nos ocupa hay partida presupuestaria y señor otero una obra como esta necesita más de cuatro años lo que pasa que yo entiendo que cuando uno ha gestionado durante poco tiempo

ustedes llegaron a españa en dos mil once tuvieron un estado prácticamente arruinado y bajaron

y aquí que ha habido una complejidad técnica enorme porque es muy compleja la obra y aparte ha habido bueno un tiempo de crisis y eso ha llevado un cierto aplazamiento de la obra bien

más razonables en su juicio señor otero las prioridades se materializan con dotación económica los gobiernos

cómo se fija si no se hace una manifestación camiseta reivindicativa no se fija con dinerito no con dotación bueno pues no es demagogia ninguna estamos hablando

y sobre lo de patadón para adelante

bueno nosotros somos más bien de mirar al futuro con visión

y hacer el pase para atrás se lo dejamos al rugby y a su parroquia que

alabo su ambición y su visión de futuro coaligados con el pnv en un gobierno que es la forma más viable en la que ustedes puedan entrar posiblemente a un gobierno eskerrik asko

rojo anderea jaitsi eta beno cuando usted

da un poco la sensación o por lo menos desde mi posición da la sensación de que precisamente lo que está haciendo es darnos la razón porque es un mecanismo recurrente en usted no yo creo que ha confundido términos y no es mi intención mi intención tampoco defender lo que

decía a ver si el irrelevante o no es irrelevante los departamentos que lleva su partido y yo desde luego evidentemente y creo que estaremos todos de acuerdo en que lo irrelevante cuando se habla de la irrelevancia

ustedes sino de los problemas que tienen de dotar de una manera suficiente económicamente para

sería ese problema y con respecto a lo de estar y no estar en el gobierno

obsesión especial porque esté o no esté el gobierno o sea el pse en el gobierno sino que yo creo que ha quedada bastante claro y por ahí yo creo que usted

no pueden comprometer esa obra no pueden comprometer es decir ustedes no pueden garantizar que eso se vaya a llevar adelante

de cuatro años como que está detectado el problema el problema desde el año mil novecientos ochenta y cinco

más o menos de cuatro años y la obra

yo lo que ha dicho es enmienda y me ha extrañado pero de verdad

hay gente que tenía traducción yo no tenía traducción pero hay gente que tenía traducción
yo le he entendido y eso así pnv psoe

aquí se han hecho modificaciones por error o sea yo vale bien vale

mira mari carmen ya pero es que no puede ser

lo he entendido mal o lo han hecho mal no lo sé pero he sido sí puede ser
lo ha entendido mal probablemente porque me dicen que la traducción ha estado bien ha estado bien por tanto lo ha entendido bien y yo me he solido confundir y
no pasa nada o sea bueno pero aquí también se ha confundido más gente y se ha modificado se ha confundido más gente y se ha modificado sí presidenta sí presidenta se ha confundido más gente y se ha modificado no perdona no no no no

no no otra cosa es que en el acta quiera constar que se ha confundido no no sí no señora presidenta lo siento pero no es así

otra iniciativa en las mismas características pero creo creo

no señora no no no no no